eta euskaditik igorritako babes politikoari eta lankidetzari en los viajes de las representaciones parlamentarias a los campos de refugiados de tinduf

en diferentes lugares de europa en sus visitas a euskadi en su propia casa en tinduf

para compartir unos breves o largos momentos con nosotros

el parlamento vasco quiere reiterarse en nuestros numerosos pronunciamientos y declaraciones institucionales aprobadas en favor de la causa del pueblo saharaui y manifiesta que este recuerdo imborrable reforzará y estrechará los lazos entre vascos y saharauis en el futuro horregatik guztiagatik

y actúa con pleno sometimiento a la ley y al derecho bigarren

alegia con pleno sometimiento a la ley y al derecho honetatik dario hain zuzen ere administrazio orok zerbitzu juridiko sendoa eduki beharra

osatu eta gaurkotzera dator el proyecto de ley que

pretende establecer las bases de un modelo propio completo integral de actuación de la administración vasca en el área de justicia un modelo completo porque incluye tanto la función consultiva como la contenciosa ambas imprescindibles para hacer efectivo el principio de pleno sometimiento de la administración pública

porque ha sido dispuesto no solamente para la administración general sino también para todos aquellos organismos de la administración institucional cuyas normas de creación y de organización

y propio porque consolida y completa una forma singular de organizarse y de hacer en el ámbito de la asistencia jurídica de la administración pública cuyas bases vienen observándose vienen practicándose prácticamente desde que se constituyó el gobierno vasco en el año mil novecientos ochenta un modelo

por una parte un conjunto de asesores jurídicos especialistas que se organizan en el seno de cada uno de los departamentos de la administración general para dar soporte jurídico a sus resoluciones y decisiones administrativas y por otra parte un grupo restringido de juristas

de la abogacía que a modo de progreso en la carrera profesional conforman un servicio jurídico central que por un lado refuerza la asistencia jurídica departamental en relación con las decisiones más especializadas del propio gobierno y por otra se ocupa también de la defensa letrada ante los tribunales de justicia

de todas y cada una de las decisiones de la administración pública vasca que son objeto de impugnación en la vía judicial sin despreciar por supuesto otras fórmulas organizativos todas ellas lícitas la experiencia acumulada en el seno de la administración

acredita que esta permite conciliar la necesaria solvencia de los servicios jurídicos hoy más necesarias si cabe que nunca con la siempre aconsejable cercanía a los responsables de las políticas públicas sectoriales pero el proyecto no

aborda también otros aspectos de la función jurídica relacionados con la representación de la administración pública ante los jueces y tribunales

de la defensa letrada ante las instancias judiciales en este punto la ley es fruto del ejercicio de la competencia prevista en el apartado sexto del artículo

referido a las normas procesales que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del país vasco

con la que la constitución reserva al estado en el ámbito de la legislación procesal creo que en torno a estas cuestiones ha habido una buena sintonía en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley

se han asumido e integrado en su texto la mayor parte de las enmiendas y de las posiciones defendidas por los grupos hasta el punto de mejorar el proyecto inicial y de poder sobre la base de ese acuerdo adentrarnos en perfilar nuevas cuestiones como lo son y me consta que así ocurre

de la misma índole los supuestos de conflictos de intereses en los que la representación y defensa en juicio

por la mera aplicación de las soluciones legales generales y habituales en este tipo de situaciones así sucederá al tratarse de la defensa de autoridades

sobrevenidas se pueda apreciar la afección directa en procedimientos relacionados con los delitos contra las administraciones públicas en tales casos insisto en que nos hemos puesto de acuerdo aquí en la cámara para que proceda la denegación de la representación y defensa por parte del servicio jurídico público el proyecto

eminentemente público en el que la representación y defensa de la administración pública ante los jueces y tribunales se encomienda en principio a una instancia pública por funcionarios públicos pese a ello su texto no impide habilitar profesionales privados externos para desempeñar esta función eso sí para cuando tal cosa ocurra se establecen mecanismos de control público como la necesidad de elaborar una memoria justificativa de la decisión y su inscripción en un registro específico de encomiendas de esta naturaleza

contempla también la hipótesis contraria esto es que entes instrumentales dependientes vinculados o participados por la administración pública y sujetos al derecho privado puedan encomendar

al servicio jurídico central del gobierno vasco durante la tramitación de la ley en la fase gubernativa hubo quien objetó que una previsión de estas características

la normativa que la garantiza no es este sin embargo el criterio del gobierno y tampoco es el criterio de la mayoría de la cámara según se ha podido comprobar

ni tampoco esto es evidente este es el criterio del legislador estatal y el de los legisladores autonómicos que han incorporado reglas similares

personalmente valoro de manera positiva esta opción creo que constituye una aportación importante al texto trabajaremos en el futuro si tiene buena acogida

una medida de mejora de la eficiencia de los recursos públicos por último quisiera hacer una breve consideración sobre la organización pública del personal en relación con las funciones de asistencia jurídica en la administración general de la comunidad autónoma de euskadi

los elementos mínimos indispensables para conseguir que se refuerce de cara al futuro la organización pública del personal del servicio jurídico central del gobierno vasco precisamente por ser el encargado de realizar las funciones consultivas más singulares y las de defensa en juicio y a tal fin contempla la creación de una especialidad reservada para el personal funcionario

de esta última función de la representación y defensa en juicio como esta previsión ha sido objeto de particular atención por parte de algunos grupos parlamentarios me parece obligado

en la actualidad los asesores jurídicos de la administración general se integran en un único cuerpo de funcionarios en el que se encuadran cerca de doscientos cincuenta

y aproximadamente treinta del tipo letrado del servicio jurídico central pues bien mientras en el primer colectivo se constata un considerable

en el escalón más alto de la carrera administrativa y hoy prácticamente todos sus puestos están cubiertos por personas funcionarias y sin embargo

necesidades derivadas de la evolución vegetativa del personal en esa preocupación se sitúa la medida de crear una especialidad

unas condiciones nuevas para el acceso al desempeño de las funciones del letrado o letrada del servicio jurídico central eso sí con el fin de procurar una estrategia

la disposición adicional del proyecto establece que todos y todas las juristas que hoy prestan servicios a la administración pública y que cuentan con una antigüedad mínima de cinco años podrán acceder a la especialidad directamente si son funcionarios

ope si hoy son interinos rentabilizando así la dedicación especializada que han experimentado

es una medida equitativa de respeto de los derechos funcionariales y al mismo tiempo una medida encaminada a garantizar una optima utilización

no desaprovechar la experiencia acumulada durante años de trabajo en unas labores especializadas que pueden ser perfectamente utilizadas y optimizadas

unidad especializada como es la del servicio jurídico central estas que acabo de resumir son las bases del proyecto que una vez aprobado por la cámara contribuirá sin duda a modernizar nuestros servicios jurídicos y a reforzar

en un momento en el que la ciudadanía exige con más firmeza que nunca el pleno sometimiento de la administración pública a la ley y al derecho

gracias señora presidenta señor lehendakari miembros del gobierno señorías buenos días a todos comparto con usted señor erkoreka efectivamente que el texto era necesario el texto que se trajo aunque un poquito tarde si me permite una pequeña

pero creo que es muy importante la labor que se ha llevado a cabo en la comisión

en un par de pinceladas es entre otras cosas para poder tomar la palabra y dar las gracias por el trabajo que se ha llevado a cabo en la comisión

y especialmente del señor orbegozo porque entiendo que ha actuado aparte de como representante del grupo como

que ha hecho una labor ímproba para admitir gran parte de las enmiendas que los grupos

a este proyecto y eso se ha hecho con múltiples reuniones de la ponencia con mucha paciencia por parte de todos los miembros sobre todo hacia mí porque a unos nos cuesta más que a otros entender las cosas y hay que releer los artículos y las enmiendas muchas veces para que al final el significado concreto

lo que quería decir el legislador nos quede claro a todos esa paciencia ha conseguido que efectivamente dentro de un ambiente de consenso y de mucho trabajo numerosas reuniones

diferentes asuntos son tres bloques los que mi grupo mantiene en las enmiendas uno muy sencillo sobre el tipo de actuaciones que los servicios jurídicos del gobierno vasco

especiales sometidas a informe y que los informes fueran efectivamente muy objetivos y basados exclusivamente en razones

de oportunidad por otra parte considerábamos que el paso a defender en los tribunales a la administración pública fuera avalado por una experiencia

de lo que es la defensa de las administraciones públicas en los tribunales todos la mayoría de los miembros de esta cámara o una importante mayoría de sus señorías son

en los tribunales muchas veces ese conocimiento del foro

francamente útiles en el resultado final del pleito por eso entendíamos que ese paso necesario darlo con una cierta experiencia en lo que es entrar en estrados y ponerse una toga que nada tiene que ver con preparar

necesarias para la defensa de los intereses de la administración y por otra parte también nos preocupaba que estos servicios jurídicos muy prestigiosos

de la comunidad autónoma vasca que podía requerir sus servicios firmar un convenio y utilizarlos para la defensa de sus intereses en juicio cuando no fueran contrapuestos

además no cobrara es decir de alguna manera evitar que se hiciera una pequeña usted ha hecho señor erkoreka referencia a ello una pequeña competencia desleal

de manera libre estos son los tres fundamentales argumentos que nosotros manteníamos

pequeñas matizaciones o diferentes puntos de vista con un texto con el que en conjunto pues estamos de acuerdo simplemente agradecer de nuevo

y darles la enhorabuena tanto al gobierno como al grupo que lo sustenta por la forma en la que ha llevado
el trabajo de esta ponencia que sí se ha reunido sí ha trabajado y ha llegado a unos consensos muy importantes muchas gracias eskerrik asko arbulo jauna euskal sozialistak ez du hitza hartu

habíamos pedido la votación separada de la disposición adicional

cuál vamos a ver si no le he entendido

dieciséis del dictamen y diecisiete y la disposición adicional y la disposición adicional la

ahora votaremos la disposición adicional solo a parte

hemos votado primero la votación conjunta a las enmiendas reservadas del grupo popular

del dictamen y de creación de un nuevo artículo la tres bis la tres bis eso estaba no y junto con eso hemos votado la disposición adicional

solo cuando votábamos conjuntamente los artículos dos cinco a siete y nueve y dieciséis del dictamen sí sí sí no en las dos en las dos

hemos votado las enmiendas reservadas del partido popular todas incluida la disposición adicional

entonces he vuelto arriba y he hecho una nueva votación sacando la disposición adicional y ahora vamos a votar la disposición adicional bai

enmienda eso hay que votar porque me ha dicho que lo saque que

hori da así que vale así que vale sí todo se ha votado hemos hecho dos votaciones

buenos días señorías lo primero pedir disculpas en lo que haya podido ocurrir respecto de esta votación bien acabamos como saben de aprobar la vigesimoquinta la décimoprimera

y aprobamos como digo una ley que a nosotros nos parecía necesaria

cuando los socialistas vemos propuestas en las que observamos posibilidades de mejorar los derechos de la ciudadanía o el funcionamiento de la administración y los servicios públicos nos empleamos a fondo para sacarlas adelante aportando lo que podamos en otros casos cuando la ley es mala de origen y no tiene arreglo

en este caso se nos ha propuesto una ley que como digo nos parecía muy oportuna de hecho el gobierno socialista dejó elaborado un texto y este texto que se nos presentaba por el gobierno actual lo hemos intentado mejorar y por eso desde que

hemos colaborado con el resto de los grupos y con el propio gobierno para hacer posible este texto que se acaba de refrendar nosotros señorías consideramos

puede conseguir mediante coordinación asesoramiento y defensa jurídica que nuestra comunidad que euskadi tenga unas normas mejor elaboradas

y como consecuencia de ello obviamente ciudadanos y sus derechos mejor defendidos como notas significativas de la ley

en la acción jurídica del gobierno que se establece el informe preceptivo respecto a cualquier participación del gobierno en sociedades fundaciones etcétera lo que llevará a evitar

a veces en la actualidad se establece efectivamente un registro público de los encargos en las encomiendas del gobierno y lo que es más importante los entes que integran la administración institucional

señorías en españa y se aclara el procedimiento para la defensa de autoridades y funcionarios estableciéndose el órgano

se defiende se defiende mejora la ciudadanía señalando expresamente que la rápida ejecución

ya que la administración no tiene otro interés más elevado que el cumplimiento de la ley y esa es la razón

votado a favor lo ha dicho todos los grupos que me han precedido

y lo cierto es que se ha mejorado la propuesta y hay que es de justicia es de justicia señalar que ha habido una actitud proactiva por parte de todos los grupos y especialmente

por parte del representante del grupo que sustenta el gobierno cuya actuación yo he de agradecer como se lo he dicho en otras ocasiones señor orbegozo los socialistas únicamente

un último esfuerzo por entender que lo podíamos haber hecho incluso algo mejor y planteábamos concretamente dos cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con dos objetivos que no era otro como decía también el consejero que garantizar

y afrontar la excesiva interinidad en los servicios que deben garantizar la seguridad

nosotros creemos que es importante que la ley comprometa ese relevo generacional permitiendo la planificación a este o a futuros gobiernos para que no sea una cuestión que quede en fin al albur en manos de la mayor o menos voluntad política de quien dirija en ese momento

una mayoría de esta cámara no comparte esta preocupación socialista por ir orientando todos nuestros servicios públicos a ese relevo generacional

damos por buenos los avances logrados yo creo que

las leyes se deben trabajar así con una propuesta aceptable con una voluntad

puedan aportar y esta ley que a pesar de que ha sido muy

mucho trabajo quiero decir que no es un ley grande no es una ley muy técnica pero nos ha costado casi un año así que señorías

las cosas se hacen mucho mejor y se acaba siendo más útiles a todos los ciudadanos cuando los grupos podemos trabajar con rigor y sobre todo con tiempo nada más y muchas gracias

voy a ser bastante breve en este proyecto

que planteamos en su día y espero que en la votación no tengamos los problemas que hemos tenido antes porque creo que no queda ninguna enmienda de ningún grupo y además lo que se vota

para que este parlamento los grupos parlamentarios pudieran recibir y pudiéramos tener acceso a los anteproyectos de leyes y de decretos

incluso a la documentación que la sustentaba en su momento el gobierno le pareció bien si bien nos dijo que la ley de transparencia iba sobrepasar con creces lo que nosotros estábamos planteando y es y los grupos del parlamento íbamos a tener

más derechos que el gobierno sea más transparente y accediéramos a esa documentación con anterioridad yo creo que en este tema el gobierno ha confundido dos cosas una lo que es la relación del parlamento con el gobierno y por eso

y otro lo que es la ley de transparencia que es que toda administración tiene que ser más transparente con los ciudadanos y los ciudadanos tienen que tener derecho a acceso a una información que hasta ese momento no tenían y la realidad de lo que nos está ocurriendo

pues yo tengo que decir que es más necesaria que nunca esta ley

este gobierno está siendo no sé si con los ciudadanos más transparente pero desde luego con el parlamento está siendo bastante menos transparente bastante menos transparente y voy a leer una respuesta que hemos recibido del gobierno

hace quince días cuando este grupo pidió que con uno de los proyectos de ley que había remitido el gobierno que faltaba la documentación que tenía que acompañar a ese proyecto de ley y no estoy hablando de anteproyectos estoy hablando de proyectos de ley y la respuesta que hemos recibido del gobierno

literal en respuesta a su iniciativa sobre los documentos no remitidos con el proyecto sobre acceso y ejercicio de profesiones del deporte en el país vasco puedo poner más ejemplos de leyes pongo en su conocimiento que en cumplimiento de compromiso de este gobierno con la transparencia y en concreto con la publicidad activa

y se encuentra o encontrará en la siguiente dirección web

lo cual quiere decir que el gobierno ha decidido que ya no remite al parlamento la documentación que está obligado por la propia ley

en respuesta al planteamiento de este grupo de que falta documentación con el proyecto de ley el gobierno nos dice

estará y luego nos dice en la actualidad se está ultimando la publicación de la totalidad de los documentos que acompañan al citado proyecto de ley labor que se prevé finalizar en los próximos días

con fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis de este gobierno a la solicitud de este grupo de que se remitan los documentos que por ley deben acompañar a todo proyecto de ley que venga a esta cámara por eso digo y repito que cuando encima estamos planteando oiga que también lo queremos con los anteproyectos

que esto no vuelva a ocurrir yo solo quiero dar las gracias a todos los grupos especialmente a la señora gallastegui que creo que ha retirado las enmiendas tiene la transaccional y con lo cual estamos todos de acuerdo en lo que hemos planteado todos los grupos estamos de acuerdo por unanimidad

y esperemos que este gobierno o el siguiente cumpla

y remita a la cámara además de publicarlo en la página web

a todo proyecto de ley y repito sin más agradecer a todo el mundo y a todos los grupos el acuerdo unánime al que hemos llegado con este proyecto de ley y esta modificación de la ley de gobierno esperar que se cumpla más que la actual ley de gobierno que décimos no se cumple y el gobierno además nos remite a una página web que ya veremos cuándo se cuelga la documentación

a ese proyecto de ley y a otros muchos y esperamos que este gobierno tiene una disposición transitoria para los próximos meses o el siguiente cumplan específicamente la ley de gobierno y la ley no de transparencia que también pero la de gobierno

porque todos los gobiernos o por lo menos yo siempre he entendido que el gobierno vasco era transparente con el parlamento vasco bastante transparente porque era su obligación otra cosa es que sea más transparente con los ciudadanos pero
es que en aras a que ahora soy transparente con los ciudadanos con el parlamento vasco dejo de ser transparente eskerrik asko damborenea jauna

la información no es una materia pasiva la información es una materia dinámica y la información es creadora de opinión

cómo no la vamos a compartir señor damborenea si el grupo parlamentario vasco en el congreso de los diputados en febrero del dos mil catorce presentó una proposición de ley de modificación de la ley de gobierno estatal ley cincuenta barra mil novecientos noventa y siete

la modificación en la exposición de motivos la modificación que se propone aparte de ser consustancial a una adecuada transparencia resulta necesaria a la hora de mejorar la labor de impulso y control

parte de su exposición de motivos y diríamos

en aquel planteamiento del grupo nacionalista en el congreso de los diputados de

que se planteaba exactamente lo mismo que recoge su proposición de ley

innecesaria repetitiva e insuficiente y a pesar de contar con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios del congreso fue rechazada en la votación por la mayoría absoluta del partido popular utilizando las palabras de la portavoz popular en aquel debate de dicha proposición en marzo de dos mil catorce

hay grupos parlamentarios con actitudes contradictorias decía

porque se considera obsoleto innecesario repetitivo e insuficiente pues aquí se plantea y

que aquí lo que se trata es de confundir la transparencia

también el grupo nacionalista presentó una proposición de ley más recientemente antes de la disolución del congreso en la que se hacía referencia al control de un gobierno en funciones por parte de las cortes no sé si eso también le suena al señor damborenea

gobierno parlamento vamos a votar juntos a favor de esta proposición de ley pero con una diferencia y la diferencia está en la voluntad política y en la coherencia política y aquí como en otros temas es muy importante la voluntad política y como se suele decir el movimiento se demuestra andando frente a la posición que he comentado del gobierno español y del partido que lo sustenta

del gobierno vasco con dos argumentos básicamente el primero el respeto a la labor del parlamento sea en funciones respeto a la labor del parlamento y en consecuencia su apoyo a todas aquellas medidas que puedan contribuir realmente a mejorar el trabajo parlamentario

con el principio de transparencia y por tanto el apoyo también a todas aquellas medidas que realmente puedan ser útiles para avanzar en este objetivo y todo ello

de facto la iniciativa está ampliamente superada por la realidad haciendo brevemente un cronológico hay un acuerdo

por el que se determinan los documentos que deberán remitirse al parlamento vasco junto a los proyectos de ley que amplía la documentación que se envía al parlamento además de lo que ya establecía la ley de gobierno de mil novecientos ochenta y uno en diciembre del dos mil quince en aplicación de la ley de transparencia estatal

por tanto cualquier ciudadano tiene acceso a ello y por otro lado además de la ley estatal de transparencia

desde el mes de noviembre del pasado año está en tramitación en este parlamento el proyecto de ley vasca de transparencia

hiru bidalketa egongo dira efectivamente con la aprobación de esta modificación va a haber tres remisiones al parlamento lehenengoa tras la aprobación por el consejero o consejera que haya dictado la orden de iniciación como establece el artículo siete punto uno de ley de procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general ya deja de ser un borrado y es lo que se convierte en un anteproyecto

cuando se envía a la comisión jurídica asesora la misma documentación que el gobierno envíe

asesora y al mismo tiempo deberá remitirse al parlamento eta hirugarrena

con el informe de la comisión jurídico asesora y la memoria de adaptación en su caso como bien decía alguna portavoz de esta cámara en el pleno de toma en consideración de esta iniciativa

esta modificación puede facilitar el trabajo de los grupos parlamentarios y contribuir a agilizar los trabajos en esta cámara lógicamente

si se recibe ante el anteproyecto aunque como hemos dicho se puede acceder a él a través del portal legegunea

más información y más tiempo para ir estudiándolo y elaborando posibles enmiendas y se podrá evitar la sucesiva y reiterada ampliación de plazos para presentar enmiendas

hemos presentado una enmienda técnica que lo único que hace es respecto a la enmienda transaccional es reorganizar los tres apartados del artículo cincuenta y seis estableciendo un criterio de orden cronológico y también hay que resaltar que una vez aprobada esta proposición de ley

por otro lado nuestro grupo ha llegado también a una enmienda transaccional con el grupo socialista en el sentido de establecer una disposición transitoria única según la cual se le da un plazo de tres meses al gobierno para que remita en un único envío al parlamento todas las disposiciones de carácter general

de la documentación referida en esta modificación legislativa

con la explicación de que era necesaria la realización de una aplicación informática para poder

al grupo socialista y finalmente nos obstante

señor damborenea agradecer el grupo popular su predisposición a llegar a un acuerdo

si es lo que presentamos en madrid y solicitar el apoyo del resto de grupos parlamentarios a las enmiendas transadas tanto con el grupo popular como con el socialista besterik gabe eskerrik asko

si yo desde el principio les dije que esta era una brillante idea del partido nacionalista vasco que nos pareció que era fantástica que ustedes planteaban que se hiciera respecto al gobierno de españa respecto al congreso de los diputados y nos pareció tan buena

para que el gobierno vasco también tenga esas obligaciones y cuando dice que aquella propuesta suya se quedó obsoleta claro porque la ley de transparencia del estado se aprobó en el dos mil catorce

nosotros la trajimos a esta cámara en mayo del dos mil catorce y estamos

junio y ahí lo voy a dejar pero lo que no me puede decir usted es que el gobierno vasco como cumple la ley de transparencia del estado

no a esto que estamos planteando algo que ya existe en la ley de gobierno la obligación de remitir a esta cámara los documentos que acompañan no a un anteproyecto como décimos

y la respuesta del gobierno ha sido que miremos en la página web que no lo manda

la que hemos recibido hace diez días y eso no es transparencia y menos si estamos hablando de anteproyectos de ley

que si usted entra en la página del gobierno vasco pues usted tiene un buscador pero si no sabe qué anteproyecto o qué

ley se está haciendo cómo la busca cómo la busca eso si es usted ciudadano pero usted cree que nosotros que el parlamento los parlamentarios los grupos parlamentarios tenemos que indagar en las páginas web del parlamento a ver qué documentación hay o qué ley se está tramitando o qué anteproyecto de ley se está tramitando usted cree que la obligación que ya tiene el gobierno por ley hoy

si además aquí le estamos diciendo oiga además queremos que en los anteproyectos también vengan y también venga esa documentación hoy el gobierno está incumpliendo la de los proyectos de ley y encima en la respuesta que les he leído

tardaremos más en colgarlo y sin embargo el proyecto se está tramitando ya en esta cámara se está tramitando en esta cámara

que vamos a dejarlo vamos a dejarlo en que hemos llegado a un acuerdo y como he dicho en mi primera intervención

si por fin si por fin se cumple y evidentemente como se dijo

si los grupos tienen acceso a la documentación antes de que venga el proyecto de ley

qué se modifica entre el anteproyecto y el proyecto que viene

pues los grupos evidentemente van a tener más información de lo que se pretendía con ese proyecto de ley o de lo que se pretende y yo me voy a quedar con que en fin pues por unanimidad

aquí todavía no la tenemos no la tenemos

nuestras propias leyes por ejemplo la ley de gobierno que recoge

en lo que queda de legislatura y la siguiente podamos

sí brevemente para comentar un par de cosas respecto a lo mencionado por el señor damborenea de acuerdo vamos a dejarlo vamos a dejarlo porque vamos a aprobarlo por unanimidad

ha salido a esta palestra a meter el dedo en el ojo al gobierno vasco como le he dicho pues tiene bastante

del gobierno español que está sustentado por su partido y sí sí que es cierto y se demuestra además el debate fue el dieciocho de marzo del dos mil catorce usted dos días después

la proposición de ley en esta cámara aun a sabiendas de que el congreso con la mayoría absoluta del partido popular había rechazado esta proposición de ley que para usted le parece tan perfecta

aquí al gobierno vasco pero que en madrid no debe ser como le decía los argumentos la señora

obsoleta repetitiva innecesaria insuficiente pero nosotros somos coherentes coherentes y lo presentamos en madrid

y también como le decía voluntad política y hablando de la voluntad política voy a terminar porque unas cosas son las palabras pero en el fondo de las palabras también

la señora portavoz del grupo parlamentario popular en el debate

que el control a priori de los anteproyectos de ley por parte de las cortes generales supondría en la práctica una injerencia del legislativo en las competencias básicas del ejecutivo

la falta de respeto al parlamento al congreso cuando el gobierno ha estado en funciones pues aquí se ve que la transparencia y esa voluntad política no es tal

miembros del gobierno isiltasuna mesedez bien según nuestro criterio a esta proposición de ley planteada por el partido popular le ha faltado
un último peldaño aunque damos por buena la reforma aprobada

intente trasladar otra impresión en este parlamento se está trabajando con gran intensidad en

y algunas son tangenciales roza el asunto señorías y a los socialistas nos gusta mantener un criterio de coherencia entre unos textos y otros y eso hicimos al tiempo que ultimábamos los trabajos de esta reforma de la ley de gobierno y ultimábamos nuestras aportaciones a la ley de transparencia y nos pareció que era una oportunidad que nos proporcionaba el proponente precisamente para profundizar en materia de transparencia

y que debía ir en consonancia con la que pudiera ser aprobada en próximas fechas o incluso en el caso de que esa ley no pueda llegar a su

que el criterio también estuviera en este texto señorías que los socialistas hemos apostado por normativas de transparencias radicales que apostamos

se facilite al máximo la información y la accesibilidad a los ciudadanos que esa herramienta sirva para ir en definitiva derribando muros de desconfianza esa fue la razón por la que hace algo más de un año pudimos devolver la ley de administración pública porque nos parecía timorata y poco ambiciosa y esa es la razón por la que la ley

de la totalidad del sector público vasco hemos hecho aportaciones que apuestan

para que haya una mayor capacidad de toda la ciudadanía al acceso a la ambición pública y que cualquiera pueda con facilidad conocer lo que hacemos

por eso creemos que no sobraba al contrario que era especialmente oportuno que si hablamos de reformar para mejorar la comunicación entre el ejecutivo y el legislativo

la accesibilidad de los ciudadanos en general a las tramitaciones de los proyectos y

nosotros creemos que nos quedamos cortos remitiéndonos al

pero no es conocida por el conjunto de la ciudadanía es conocida fundamentalmente por especialistas y la verdad es que en estos momentos no podemos invitar a la ciudadanía a un tour por todas las páginas webs del gobierno y se lo digo a conciencia y con

de este tipo es para que fuera la puerta de entrada natural a cualquier persona a cualquier cosa que buscara dentro de los muchos espacios del gobierno como ustedes ya saben porque hemos hecho más de una pregunta y creo que ya hemos hablado de este asunto hoy en día hay que hacer un recorrido de imaginación para saber por dónde se cuelga las órdenes del día los acuerdos adoptados que un día están en un sitio

no nos gustan y simplemente creemos que la transparencia tiene mucho que ver con sobre todo hacer fáciles las cosas

con la que seguiremos trabajando en la ley de transparencia y es una lástima pero

y en su caso haber facilitado como digo el acceso de la fácil con un a la ciudadanía a todos los asuntos

el sector fundacional ha crecido de manera exponencial

las cifras oficiales hablan por sí solas las más de seiscientos fundaciones inscritas en el registro de fundaciones del país vasco suponen

con un peso del cero coma nueve por ciento en el pib de la comunidad autónoma de euskadi

el sector ofrece también una vertiente cualitativa que no puedo pasar por alto en esta intervención en los últimos lustros

que desde el ámbito de la tecnología de la investigación de la cooperación al desarrollo de la cultura o desde el ámbito también de la intervención social inciden en una medida que no conoce precedentes en el desarrollo de servicios para la comunidad a esta creciente complejidad del fenómeno fundacional

ante el pleno y lo hace desde una vocación modernizadora que busca mejorar los cauces de interlocución entre las fundaciones y la administración pública simplificar los procedimientos y habilitar

similares a los previstos para otros sectores que actúan en áreas de interés general el proyecto sigue encomendando el gobierno de las fundaciones a un patronato cuya estructura debe en principio ser colegial aunque mantiene una especialidad de la legislación fundacional vasca según la cual se admite la posibilidad de que la persona fundadora designe

unipersonal por otra parte incorpora una novedad reseñable en torno al sentido de la inscripción de las personas que integran dicho órgano de gobierno

una inscripción declarativa sujeta a plazo con el fin de reforzar la seguridad jurídica con respecto a los terceros de buena fe que acceden al registro

su actuación personal a la información suministrada por aquel por lo que respecta al patrimonio fundacional la reforma legislativa se ha inspirado en un principio de máxima simplificación administrativa con el fin de facilitar que todo ciudadano o ciudadana

los trámites administrativos que debe cumplimentar en esta misma línea se han suprimido al máximo los procedimientos autorizatorios

una materia muy sensible para establecer en su lugar la figura de la declaración responsable en consonancia con lo que ha venido estableciendo

europeo y del consejo relativa a los servicios en el mercado interior como contrapartida a esta reducción de las cargas administrativas se refuerza la función de supervisión del protectorado permitiéndose

sobre los actos de disposición patrimonial sobre el régimen de funcionamiento de las fundaciones eminentemente privado pivotan una serie de principios de actuación entre los que destacamos por la importancia que revisten de cara a reforzar la credibilidad de este tipo de organizaciones

de buenas prácticas y códigos de conducta así como la transparencia y la imparcialidad y no discriminación en relación a las posibles personas beneficiarias la obligación que por excelencia recae sobre las fundaciones es la de presentar anualmente la rendición de cuentas del ejercicio anterior el gobierno vasco había llamado la atención sobre el elevado porcentaje de fundaciones que venían incumpliendo este deber y también sobre la necesidad de adoptar medidas coercitivas que sin llegar a ser sancionadoras compiliesen a las fundaciones al cumplimiento de esta obligación como digo básica y esencial el proyecto se hace eco de esta necesidad previendo el cierre registral como reacción directa e inmediata ante la falta de presentación de las cuentas

se prevé la publicación del listado de fundaciones incumplidoras de esta obligación así como de aquellas otras que habiendo presentado las cuentas lo hayan hecho de manera

en esta misma línea de rigor y transparencia en todo lo relacionado con la información económico contable se ha considerado conveniente ampliar la obligación de auditar de manera perceptiva la gran mayoría de las fundaciones manteniendo sin embargo la exención

de más reducida entidad por lo que respecta a la liquidación de las fundaciones constituidas por personas jurídico públicas el proyecto prevé la reversión del remanente si no en su totalidad sí al menos en proporción

aportación que haya podido ser realizada por dichas instituciones con ello se posibilita en defensa del interés público que la aportación pública para fines de interés general pueda volver a manos públicas el mantenimiento del sentido

ciertamente complejo y esto ha sido así entre otras cosas porque la tendencia general en la administración pública es precisamente la contraria

la salvaguarda del interés de los terceros que confían en la publicidad y en la veracidad del registro impide que este pueda nutrirse

su función pública por tanto en buena parte depende de la verosimilitud de la credibilidad de la certeza de los datos que obran en la misma

a facilitar que las fundaciones puedan hacer sus trámites de forma telemática como muestra del compromiso del gobierno por la modernización de los registros

el proyecto por otra parte hace también referencia a las fundaciones de naturaleza especial que disponen de un marco regulador específico

las disposiciones generales de la materia fundacional porque el legislador ha decidido que precisamente de adquirir esta forma jurídica la de fundación se trata de las denominadas fundaciones del sector público y de las más recientemente reguladas fundaciones bancarias

y con las asociaciones representativas del sector a través de la remisión de la información que sea necesaria relativa al ámbito de competencia de las fundaciones todo ello para un mejor y más eficaz desarrollo de las respectivas atribuciones públicas además se crea también en el proyecto el consejo vasco de fundaciones como órgano de naturaleza consultiva que se erige en foro de encuentro y participación de las

la implantación en el capítulo cuarto del proyecto de un régimen sancionador

pretende ser una garantía del cumplimiento efectivo de la voluntad fundacional y de un adecuado funcionamiento de las fundaciones esa es su finalidad ese es el objetivo que fundamentalmente persigue este capítulo junto al mismo se ha considerado necesario también introducir otras formas de canalización de conflictos como el de la mediación por ejemplo de modo que

sea siempre la última ratio en casos especialmente sustanciales especialmente graves y reiterados en definitiva la nueva ley de fundaciones será una norma imprescindible que va a aportar

a la administración y a la ciudadanía en general incorporando

todas las normas aplicables en la materia y al mismo tiempo introduciendo modificaciones de índole técnico jurídica que facilitan el cumplimiento de las obligaciones legales

así como de la heterogeneidad de las entidades objeto de regulación hay que tener en cuenta a este respecto que efectivamente estamos hablando de una ley que regulará

de muy diferente dimensión y naturaleza aunque todas ellas obedezcan a la forma fundacional en el texto que hoy analizará el pleno de la cámara

agradezco sinceramente su esfuerzo y dedicación y confío en que la tarea compartida sirva para ofrecer a los operadores jurídicos

una regulación actualizada adecuada y suficiente para garantizar el derecho de fundación

la protección de los intereses generales a los que el ejercicio de este derecho debe inevitablemente servir eta besterik gabe gaurkoari dagokionez

consejeros estando básicamente de acuerdo con la mayor parte del texto me centro

registramos un total de diez enmiendas parciales a este proyecto de ley de las cuales dos fueron finalmente transadas o incorporadas al texto y ocho fueron rechazadas con la primera de las enmiendas con la enmienda número uno pretendíamos la modificación del artículo cuatro punto uno

entre los que queríamos que fuesen incluidos la promoción del voluntariado y la defensa de la tolerancia

se ha aceptado esta propuesta de upyd con la enmienda número dos al artículo cuatro punto dos en el que se hacía referencia a quién debe beneficiar la actividad fundacional proponíamos también una reforma

no era necesaria una referencia expresa a las empresas cuando pueden existir otros beneficiarios como pueden ser jubilados niños u otros colectivos

físicas o jurídicas los criterios de selección de las personas beneficiarias deberán ser objetivos e imparciales con la enmienda número tres al artículo siete punto uno pretendíamos eliminar las fundaciones públicas se proponía la modificación del artículo para hacer desaparecer

quedara el texto redactado de la siguiente manera podrán constituir fundaciones tanto las personas físicas como las jurídicas privadas salvo que sus normas reguladoras lo contrario no estamos de acuerdo con la existencia de fundaciones de carácter público ya que sus funciones pueden y deben ser desarrolladas directamente por la administración

las instituciones finalmente esto no se ha aceptado y por lo tanto mantenemos esta enmienda pensamos que sería la forma más eficaz y más eficiente de utilizar el dinero público por lo tanto nos oponemos

sí fue aceptada la única que fue aceptada junto con la enmienda número uno se reduce el plazo de comunicación al registro de fundaciones del país vasco

y b con esta enmienda se pretendía reducir la cantidad a partir de la cual se realizarían las auditorías externas en las fundaciones inscritas en el correspondiente registro tanto en lo relativo al balance como al volumen de actividad

reducir esas cuantías de dos coma cuatro millónes a uno millón de euros no ha sido aceptada y por lo tanto lo mantenemos

pretendíamos ampliar los mecanismos mediante los cuales se lleve a cabo la tramitación de los procedimientos en el registro hoy protectorado de fundaciones pudiendo utilizar otros mecanismos más allá de los meramente electrónicos aunque estos se usasen

preferente aunque estamos de acuerdo en que se debe avanzar decididamente hacia la administración electrónica y a la progresiva desaparición del papel nos parece

o no utilicen adecuadamente los sistemas telemáticos con la enmienda número siete proponemos la supresión de toda referencia a la comisión asesora nos parece innecesario este órgano porque ya se crea en la sección cuarta de esta ley artículo sesenta y uno y sesenta y dos

el consejo vasco de fundaciones como órgano asesor y con representación del sector y de especialistas y finalmente las enmiendas ocho nueve

a la necesidad de suprimir de que no existan fundaciones de carácter público estas son las diez enmiendas que presentamos en su momento como digo

ocho quedarían pendientes nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho cuando ha hecho la exposición o la presentación de este proyecto de ley porque efectivamente considero que esta ley es necesaria

afecta a un sector muy importante en nuestra comunidad autónoma

se hacía necesaria el proyecto que ustedes han presentado creo que es bueno pero que era susceptible de ciertas mejoras por parte de todos los grupos y eso se ha visto

las del grupo popular en mayor cuantía pero también eran muy numerosas las enmiendas presentadas

el resto de los grupos en ese aspecto sí le doy la enhorabuena mi crítica si me lo permite breve y muy moderada es por el tiempo en la presentación de la norma y así como en el punto primero del orden del día cuando hablábamos del proyecto de ley regulador de la ordenación de los servicios jurídicos una ley que llegó con un año

presentado no ha tenido incidencia porque ha dado lugar a que exista un debate intenso sosegado y que

de manifiesto todos los portavoces que han intervenido en este caso el tiempo sí que ha jugado una mala pasada a la ley esta ley tenía que haber llegado en el segundo semestre del dos mil catorce y llegó en el segundo semestre del dos mil quince y realmente no ha existido ese debate sobre muchos de los aspectos que tiene la ley muchos y muy complejos es una ley muy técnica y yo creo que eran muy necesarias muchas explicaciones de la voluntad de las partes a la hora de enmendar y de la voluntad del gobierno a la hora de admitir y le vuelvo a dar la enhorabuena porque creo que se han admitido

de las posturas disconformes con el proyecto presentado por parte de todos los grupos mediante sus enmiendas y que el gobierno

admitir muchas pero estoy seguro de que si se hubiera celebrado la ponencia y esto ya sé que no es responsabilidad suya conforme lo prevé el reglamento y se deben realizar las ponencias es decir

periódicas viendo artículo por artículo oyendo la opinión no solamente del gobierno

habríamos llegado a un acuerdo más cerrado y por eso precisamente nosotros hemos mantenido un elevado número de enmiendas

en esa ponencia que solamente tuvo una reunión que sorprendentemente duró

al menos a nuestro grupo se nos comunicó que el texto estaba cerrado y que lo que veníamos a hacer era aprobar el dictamen de la ponencia y que ya pasaba a comisión sí es cierto que anteriormente hubo contactos con el gobierno exclusivamente perdón a través del grupo nacionalista

el poder debatirlo en el seno de la ponencia debatirlo porque se hubiera llegado a muchos acuerdos porque yo estoy seguro que hay cuestiones por eso hemos mantenido muchas enmiendas

que el resto de los grupos habrían admitido a mí me sorprende mucho que el partido socialista o el grupo bildu no hayan admitido enmiendas

a la transparencia de las fundaciones yo creo que tenemos que ser muy exquisitos precisamente en lo que es la gestión del dinero público

que tenemos en esta comunidad a las que le va a afectar directamente esta ley

público y aquí yo creo que es muy importante la

transparencia y en este caso me parece que nos vamos a quedar en la traslucidez y me explico señor erkoreka yo creo que si hubiéramos tenido la oportunidad de debatir en la comisión habríamos

a las del registro mercantil y de las sociedades es decir si usted y yo montamos mañana cuando acabe esta legislatura obviamente una sociedad juntos al día siguiente la inscribimos en el registro mercantil y eso es público y se va a ver qué parte

es propiedad de cada uno cuál es la evolución económica de nuestra sociedad qué impuestos pagamos qué facturación tenemos y eso lo puede ver cualquier ciudadano accediendo al registro mercantil por métodos sencillísimos

no lo hemos reflejado así y teníamos la oportunidad de hacerlo y si se hace para entes mercantiles por qué no para las fundaciones que gestionan intereses públicos y dinero público en la mayoría de las ocasiones

a mí me hubiera gustado convencer a los grupos de la necesidad de prohibir o dificultar

una fundación para que los patronos los fundadores puedan beneficiarse de la actividad de la fundación

trabajar para ella ni ellos ni las personas afines ni sus parejas ni sus cónyuges ni las personas cercanas padres hijos socios etcétera etcétera eso yo creo que en un debate sosegado en la ponencia habríamos llegado a un acuerdo porque pienso sinceramente

administrativo el silencio de la administración en los pocos puntos en los que aparece en la ley es negativo es decir las directivas europeas sobre el silencio administrativo son clarísimas

debe ser positivo salvo en aquellos casos en los que haya un interés general que justifique que sea negativo yo aquí no veo ningún interés general que permita yo sé que es más cómodo para la administración y entiendo perfectamente a los legisladores

quienes se van a ver afectados por ese cambio en el sentido o en la interpretación de ese administrativo otras cuestiones como el consejo vasco de las fundaciones pues nosotros los eliminábamos de la ley porque pensamos que era un órgano que no era necesario porque realmente está prácticamente formado al cien por ciento por el gobierno

y no es necesario crear más administración entiendo que hay que adelgazarla y no generar

más órganos más consejos pero seguramente en un debate sosegado si la intención era otra

seguramente me habrían convencido de cuál era la intención del legislador y también hemos mantenido señor erkoreka una serie de enmiendas a la exposición de motivos porque

pero sí tienen entiendo es mi opinión sí que tienen un valor como instrumento jurídico para interpretar las normas y cuando cada vez más a menudo se empieza a ver en las exposiciones de motivos de esta ley y de otras muchas leyes de este parlamento y de otros parlamentos

congreso de los diputados nos encontramos con que en las leyes en las exposiciones de motivos se hacen desde

opiniones particulares soflamas políticas yo creo que hay que ser un poquito más serio porque los juristas tanto los de la administración como los letrados como sus señorías cuando aplican las leyes utilizan las exposiciones de motivos para conocer muchas veces el sentido

su autor el legislador por eso mantenemos esta serie de enmiendas a la totalidad pese a que ayer

retiramos en torno a veinte enmiendas para la misma para evitar que se produzcan problemas a la hora de las votaciones nosotros no tenemos

que ha mantenido el grupo popular y sí solicitaríamos la votación aparte señora presidenta yo le aviso con tiempo

presentadas por el grupo socialista como no tuvimos opinión y en la ponencia

la oportunidad de mostrar cuál es nuestra opinión y cuáles son nuestras dudas hacia la posibilidad

para poder abstenernos porque tenemos dudas de su viabilidad muchas gracias eskerrik asko

gracias presidenta hoy traemos a este pleno la aprobación definitiva del dictamen en relación al proyecto de ley de fundaciones del país vasco

un papel muy importante en el fomento de actividades de interés general dentro de la vida social vasca pero la norma actualmente existente debía ser nuevamente elaborada

y a la ciudadanía adaptándolo a los nuevos tiempos creo necesario poner de manifiesto en mi intervención el

grupos parlamentarios que han mejorado el proyecto de ley inicial y que ha quedado enriquecido con las aportaciones realizadas a través de las distintas enmiendas

se ha llevado este trabajo bastante a través de diferentes reuniones y aportaciones por los grupos que han querido efectuarlo así

de dicho trabajo hemos conseguido que todas las enmiendas que nosotros habíamos

aceptadas o han sido transadas con lo cual no queda ninguna enmienda viva para ser aprobada en este pleno porque todas han sido

texto que hoy hemos aprobado por ello votaremos a favor del dictamen y en contra de las enmiendas que han quedado sin acordar por parte del grupo popular

hemos votado en contra de upyd que son las únicas que han llegado a este pleno en mi intervención voy a referirme

de las aportaciones que por parte de mi grupo se han realizado no todas porque no da tiempo a todas ellas

en la ley de fundaciones con la finalidad de que actúe como mecanismo disuasorio de las conductas contrarias a las obligaciones administrativas y como medida generadora también de confianza para quienes contribuyen a la financiación de estas entidades y para contribuir también a que el proyecto fundacional se desarrolle conforme al interés general y a la voluntad del fundador y para ello incorporamos un nuevo capítulo el capítulo cuarto marcando los artículos sesenta y seis a sesenta y cuatro

punto importante también es que con carácter previo y obligatorio antes de iniciar por parte del protectorado cualquier procedimiento sancionador se ha de llevar a cabo una mediación que se regula en el artículo sesenta y ocho del proyecto de ley

de alguna infracción requiriendo con carácter previo a esa fundación y dándole un plazo para que subsane esa irregularidad y solamente

en una segunda fase se utilizaría la potestad sancionadora con lo cual ninguna fundación se puede encontrar sin haber tenido comunicación con carácter previo con que le puede llegar y no haber tenido conocimiento de ello porque eso estaría incumpliendo lo establecido en la ley que establece con carácter obligatorio el tener que pasar primero por esa mediación requerimiento lo cual pone de manifiesto la intención de querer cumplir y conseguir que se cumplan las obligaciones más que

de este procedimiento sancionador que no era en ningún caso también tengo que poner de manifiesto que nosotros

llegar a un acuerdo transaccional se incorporó como dos párrafos nuevos al artículo sesenta y tres

la propuesta para evitar consecuencias que las modificaciones que esta ley pudieran tener en empresas participadas por la administración pública como podían ser la fundación hobetuz y así en la transacción se incluyeron dos nuevos párrafos que permiten a la propia administración poder nombrar

o organizaciones empresariales también poner de manifiesto en el ámbito de la igualdad que se ha incluido la igualdad de género entre los principios de actuación y funcionamiento de las fundaciones en el país vasco así como también la obligación de elaborar planes de igualdad en el artículo

de esta nueva ley que no existían en el texto original he destacado estos como más importantes nosotros

le dábamos mucha importancia pero también incorporamos puntos que también fueron aprobados o transados en definitiva creemos que el texto que hoy ha sido aprobado después de este profundo trabajo elaborado por los distintos parlamentarios es mucho mejor técnicamente que el texto original y estamos satisfechos por el trabajo de mejora realizado donde mi grupo parlamentario los socialistas vascos han incluido importantes aportaciones que en esta relación nada más y muchas gracias

gizartearen egungo eskakizun eta beharrei erantzunez ere se trata también de mejorar los cauces de interlocución entre la administración pública y las fundaciones a la vez que aportar seguridad jurídica tanto al sector como a la administración y a la propia ciudadanía se reducen los trámites administrativos que la ciudadanía debe cumplimentar y se refuerza la función de supervisión

en cuanto a los principios de actuación resaltar los de buenas prácticas y códigos de conducta la transparencia imparcialidad y no discriminación

y es por la defensa del interés general en consonancia

así mismo se facilita la realización de los trámites de forma telemática se implanta un régimen sancionador pero se introduce la mediación previa eta azkenean

legearen arabera y ya no me voy a extender porque creo que está todo dicho y para finalizar simplemente

tanto al sector como a los grupos por sus aportaciones y en especial por la disposición

las representantes del grupo socialista y del grupo eh bildu

que ha mostrado algún otro grupo cuyo representante ha hecho un baldío esfuerzo para justificar su actitud eskerri asko eskerrik asko

sí muchas gracias presidenta y muchas gracias señor arieta a su referencias a mi persona y al gran trabajo político que realizo en este parlamento

lo reconozco soy insistente y decidido defiendo las ideas en las que creo prefiero ganar debates que votaciones

en lo accesorio y firme en lo esencial ahora les toca reconocer a ustedes que esto que les acabo de decir es básicamente cierto y que producto de mi insistencia ustedes han llegado a cambiar de opinión en algunas ocasiones lo cual es un éxito

y no tanto de un servidor han sido varias las ocasiones en las que upyd ha pedido tanto en el parlamento vasco como en los congreso de los diputados y en otras instituciones

por ejemplo el doce de junio de dos mil catorce upyd defendió en el pleno de este parlamento una iniciativa parlamentaria que lo proponía

a que en el próximo proceso de reforma constitucional se eliminaran los supuestos de aforamiento previstos en la constitución

todas las prerrogativas parlamentarias sin perjuicio de lo anterior y mientras ese proceso de revisión constitucional se produce en el plazo máximo de seis meses impulse todas las reformas legales necesarias a fin de suprimir en el ámbito de sus competencias

en las distintas leyes proponíamos también instar al gobierno vasco y que se comprometiera él mismo es decir el propio parlamento a impulsar en el ámbito de sus competencias todas las reformas legales que fueran necesarias con el objetivo de eliminar todos los supuestos de aforamiento existentes actualmente en la comunidad autónoma

y propusimos también instar a las juntas generales de los territorios históricos y a las propias diputaciones a impulsar todas las reformas normativas con ese mismo objetivo tal propuesta no recibió el apoyo de ningún otro grupo parlamentario y por tanto decayó del mismo modo parecido que iniciativas semejantes decayeron antes

propio congreso de los diputados en aquella ocasión en la que defendimos en el congreso de los diputados la supresión de los aforamientos todos los grupos criticaron contundentemente

upyd y consideraron innecesaria la idea de suprimir los aforamientos existentes en españa en aquel caso nos atacaron y nos acusaron de hacer demagogia y de hacer populismo y de llevar a cabo adelante la antipolítica ese día doce de junio de dos mil catorce se aprobó la enmienda presentado por el grupo socialista votada favorablemente por el grupo proponente y por upyd que decía los siguiente

del régimen de garantías de los cargos públicos y sus límites una enmienda claramente insuficiente en opinión de nuestro grupo aunque el compromiso de examinar y reflexionar sobre la cuestión en fin fuera algo más que nada en su momento

que vilipendió la propuesta de upyd planteada en su momento en el congreso afirmaba en una entrevista lo siguiente proponemos pasar de diecisiete mil seiscientos veintiuno que hay en españa a veintidós admitiendo de ese modo en parte los planteamientos expuestos por nuestro partido político unos pocos meses antes y que él críticamente y duramente criticó durante los últimos tiempos las cosas

en euskadi y en el conjunto de españa si cuando upyd propuso la supresión de los aforamientos el resto de partidos políticos tildó la propuesta de demagogia populismo o anti política ahora en general se ve con buenos ojos

ahora incluso incluyen esta propuesta en sus programas electorales como una medida moderna necesaria y de regeneración de la democracia son cosas que pasan la última vez que el asunto se debatió fue apenas hace un par de meses en el senado español sin que finalmente se aprobara nada efectivo

consideramos apropiado traer este asunto en primer momento en el pleno de control y finalmente a través de esta moción a este pleno el señor erkoreka me definió hace unos cuantos días de cronista

parlamentario creo que teniendo en cuenta que upyd tiene un solo representante parlamentario hago todo lo que debo y todo lo que puedo no va hoy a ser yo quien efectivamente traiga aquí una reforma concreta de la constitución española o del estatuto de gernika para la supresión de los aforamientos lo más razonable es el buscar el mayor consenso posible

para defender esa posición política y que sea el propio gobierno de españa el propio gobierno vasco quienes lleven a cabo las actuaciones precisas para proceder y llevar a cabo esas reformas en efecto la institución del aforamiento

sin precedentes al calor del desarrollo del estado de las autonomías y de la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones del estado comenzando por la justicia pero continuando con otros ámbitos como los organismos supuestamente independientes como los entes reguladores defensor del pueblo y todos sus homólogos de ámbito autonómico antes de nada hay que recordar que el aforamiento consiste en que determinados procedimientos judiciales deban ser conocidos cuando afecten a ciertas personas por un órgano judicial diferente

previsto por la ley por ejemplo según el artículo setenta y uno punto tres de la constitución en las causas contra diputados y senadores será competente la sala de lo penal del tribunal supremo y el artículo ciento dos punto uno extiende la prorrogativa

y sus ministros por qué décimos que el aforamiento es un privilegio en primer lugar el aforamiento supone una excepción al principio de igualdad las explicaciones que dio en su momento el tribunal constitucional

de mil novecientos noventa y siete son ciertamente endebles decía que la prerrogativa de aforamiento actúa como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional

si no fuera porque la realidad demuestra que el efecto conseguido es precisamente el contrario pues los altos tribunales del estado como el tribunal supremo o los tribunales superiores de justicia son los más susceptibles de politización habida cuenta de que en el nombramiento de sus magistrados interviene directamente el consejo general del poder judicial a cuyos miembros nombran a su vez los partidos políticos mediante un cálculo

de reparto de cuotas además el aforamiento conlleva que tan pronto como le conste al juez de instrucción que está investigando un delito cuya responsabilidad pueda imputarse a un aforado deberá remitirla el órgano jurisdiccional competente perdiendo así el caso aunque existan otros imputados no aforados salvo que sea posible el enjuiciamiento separado algo poco habitual la figura del aforamiento retrasa

y provoca disfunciones y una sensación entre la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos y nosotros queremos que la justicia sea igual para todos

igualmente tratados ante ella ostentar la condición de aforado también tiene alguna consecuencia negativa ciertamente como la perdida en algunos casos del derecho a la segunda instancia lo cual es especialmente perjudicial para todos aquellos no aforados que se ven arrastrados por el imputado aforado a un tribunal distinto del suyo natural que le correspondería

de competencia todo lo anterior sería en nuestra opinión suficiente para desterrar la figura del aforamiento de nuestro ordenamiento jurídico aunque tal cuestión afectara tan solo a una persona pero es que no afecta a una sola persona afecta a miles de personas en españa en españa miles de personas somos aforadas

mientras que en los países de nuestro entorno apenas hay aforados en algunos países hay diez en otros tres en otros dos y en otros muchos no hay ni un solo aforado y es que nuestro país no solo están aforados como hemos visto los parlamentarios y senadores de la nación ante el tribunal supremo sino que

han hecho lo propio las distintas comunidades autónomas extendiendo dicho privilegio a los parlamentarios autonómicos presidentes autonómicos y miembros del gobierno regional a tales personas cabe añadir un inmenso número de personalidades públicas tales como los vocales del poder judicial los magistrados del tribunal supremo y de la audiencia nacional el presidente del tribunal superior de justicia

el defensor del pueblo los adjuntos del defensor del pueblo los consejeros del tribunal de cuentas del consejo de estado los generales del ejército los almirantes el fiscal togado

local unos aforados al tribunal supremo otros a los tribunales superiores de justicia y otros a las audiencias provinciales obviamente

son igual de graves sin duda los más perjudiciales son aquellos que aceptan a los cargos de designación política en nuestra opinión no solo por la mayor relevancia pública

se percibe por la ciudadanía y esto es importante como un privilegio creado a fin de proteger a tales cargos de posibles imputaciones por corrupción política aumentando la sensación de impunidad de la clase política y el desapego de la ciudadanía

de que no todos los supuestos son igual de graves ninguna razón de peso justifica

se compara con la existente en otros países de nuestro entorno

de la república francia en el cual existen en torno a diez aforados

o reino unido donde no hay un solo aforado en la actualidad por esto planteamos en su momento la misma moción que defendimos hace dos años porque pensamos que hay que dar los pasos precisos para suprimir todos los aforamientos existentes en euskadi y en españa ciertamente y a pesar de que la moción presentada por upyd

hace dos años afortunadamente las enmiendas de los diferentes grupos han sido claramente distintas especialmente en algún caso todos ellos de un modo

al menos a coincidir en algunos de los argumentos expuestos por upyd por eso vimos la posibilidad cierta de que finalmente pudiéramos llegar

que pudiera recibir el apoyo de la mayoría de los grupos parece ser por lo que me dicen que finalmente esta transaccional que hemos firmado con el grupo socialista podría llegar a ser apoyada

la mayoría de los grupos y finalmente saldrá adelante la enmienda de transacción será repartida

lo que se propone es instar a las cortes generales instar al gobierno de españa e instar al gobierno vasco

incluidas las constitucionales para que la figura del aforamiento deje de existir en españa nuestra posición política defendida en el tiempo es que

algunos de los grupos defiendan cosas distintas nuestro posicionamiento es ese pensamos que todos los ciudadanos tienen que ser igualmente tratados ante la justicia que no puede haber diferencias que la justicia es igual para todos y que por lo tanto figura anacrónica y que pensamos es un privilegio debe ser cuanto antes suprimida nada más y gracias a la señora gallastegui

y al resto de grupos que finalmente vayan a votar a favor de esta enmienda nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

no me lo haga así no me haga esos gestos porque bueno porque aquí puede haber una ingerencia muy importante muy muy importante

a lo que hoy estamos tratando eta gaur tratatzen ari garena da

gracias presidenta bien buenos días de nuevo señorías

qué pero le quiero decir desde luego que con independencia de que personalmente me parece que la enmienda de totalidad que había presentado el partido

y concretamente la enmienda que presentamos me parecía muchísima más adecuada muchísimo más acertada

efectivamente señor maneiro como usted empezaba su intervención y hemos discutido sobre el aforamiento varias veces en este parlamento y hemos venido a convenir que es una situación

y que el núcleo del debate no debe ser solamente el aforamiento es decir el lugar en el que debemos ser enjuiciados sino impedir por todos los medios

hace dos años esta cámara efectivamente avaló la posición que trajimos los socialistas que era abrir una reflexión

públicos y también sus límites efectivamente fue un aval limitado porque en realidad los respaldamos solamente los proponentes de ese texto

fíjese que no me quedó muy clara la posición yo creo recordar que por parte de bildu se habló fundamentalmente

de la excepcionalidad de la audiencia nacional que podíamos volver a ella a lo largo de este debate sobre todo porque hemos tenido recientes

cuál era la posición del partido popular en cualquier caso parece que las cosas han cambiado y efectivamente han pasado dos años y las cosas han cambiado y han pasado cosas ha pasado que se ha producido esa reflexión entiendo yo que se ha producido esa reflexión de la que hablábamos

quiebra rompe y es una excepción como efectivamente se ha venido a decir hoy

es una excepción del principio de igualdad ante la ley y que todas las razones conocidas por todos que podían avalar antes que una institución como el aforamiento existiera

suficientes y proporcionales para conseguir las finalidades que se pretenden en este tiempo también hemos visto muchas otras cosas hemos visto quien hay que quiere renunciar al aforamiento

y hemos visto también a quienes se refugian en el aforamiento para sentarse en un banquillo en diferido para dilatar el momento del juicio oral amparándose en la inmunidad con la pretensión de transformarla en impunidad por el simple paso del tiempo

señor maneiro los socialistas vamos a reconocerle que sí es oportuno que hablemos de esto y que tenemos datos nuevos de hecho fuimos los socialistas quienes efectivamente como usted

que me ha gustado mucho su intervención se parece muchísimos a la intervención de nuestro representante senador

y tenemos como le digo la consideración de que es efectivamente necesario que hablemos de esto y

este debate de nuevo en la comisión constitucional del senado y lo hicimos por la vía que hay que hacerlo y es la que planteábamos en nuestra enmienda que no es otra que la reforma constitucional en la que entre otras cosas

de los aforamientos y también lo décimos aquí aquí nos toca hacer la reforma estatutaria luego no creo que haya ningún tipo de injerencia

de españa me lo aclara usted luego en su caso es decir a esos los dejamos aforados

en la comunidad autónoma del país vasco es decir en este parlamento la verdad es que aquí ahora todo el mundo se le llena la boca con este tema de los aforamientos y me parece muy bien porque yo estoy convencida de que todos los que sentamos en esta cámara y que además nos vamos a presentar a las elecciones que representamos a partidos que se van a presentar a las elecciones

porque esto no es más que cuestión de voluntad política pero a mí se me ocurre explicarles por ejemplo una situación que se puede dar y

renunciar a nuestro aforamiento solo con voluntad

al final probablemente lo haríamos en determinadas ocasiones y le voy a poner un ejemplo a nosotros los ciudadanos nos pagan un sueldo nos pagan un sueldo y yo creo que sinceramente no nos lo pagan para que estemos todos los días de tribunal en tribunal

una organización que se autodenomina sindicato pero que el juez ha considerado la justicia ha considerado que es una organización criminal como es manos limpias se les ocurre intentar chantajear

así que vamos a llevar el debate a su sitio el sitio de este debate son las garantías cómo garantizamos que determinadas funciones como

o la de los determinados en fin funcionarios públicos

esa es la principal cuestión y también es cierto

estamos totalmente de acuerdo porque si efectivamente hay algo como decía el señor

y como decía también nuestro representante en el senado cuando presentó esta iniciativa es que si hay algo que está hoy claro y además es pacífico pero absolutamente pacífico es que la ciudadanía percibe la institución del aforamiento procesal como un privilegio

que crea una distancia entre esa ciudadanía y sus representantes sobre todo cuando acude algunas situaciones injustificables de

por el interés de agotar los últimos recursos para evitar una investigación

efectivamente como le decía antes señor maneiro hablamos hace dos años y yo creo que lo que le dije hace dos años sirve ahora mismo para lo que le voy a decir

ahora yo creo que hemos abierto este debate y hay que estar de acuerdo y ponernos de acuerdo por eso hablamos de establecer cuál va a ser el sistema de garantías en este caso de los representantes públicos para poder ejercer bien su trabajo y creo que lo máximo que podemos hacer es intentar consensuar y concitar un acuerdo porque este tipo de reformas necesitan absolutamente un consenso digamos que máximo

cómodo en este tipo de reformas para poder acceder en fin para poder conseguir lo que se quiere que es efectivamente que la ciudadanía no perciba una distancia entre

y también le dije en aquella ocasión que esto de la reflexión no era solamente un brindis al sol y de hechos las cosas están cambiando sustancialmente porque se está planteando por parte de los grupos políticos una reforma constitucional

aplicarse solamente al tema del aforamiento sino también a la aplicación de la justicia en general que creo que tendremos ocasión de hablar próximamente porque usted mañana tiene una moción en ese sentido que seguro deriva en otra moción como esta tiene una interpelación perdón y

señor maneiro usted sabe que a todo esto le tenemos que dar un encaje adecuado que pasa por la reforma constitucional señor agirrezabalaga es que no puede pasar por otra manera y aquí

para terminar señorías con claridad creemos que el aforamiento en que se enjuicia a los políticos en tribunales distintos a los ordinarios ha sido una figura que ha tenido una razón de ser

de una manera de un lado de una forma perversa y por otro el problema es que tampoco se consiguen muchas de las garantías que con esta figura se buscan como esta es la realidad lo que tenemos que hacer es revisar el sistema de forma legal cambiando las leyes que haya que cambiar que son normas que requieren

y esos cambios que se requieren los podemos empezar a mover rápidamente dentro de tres

planteemos y dentro de cinco meses va a haber otras aquí o de cuatro meses planteemos todas estas reformas estudiadas ya para llevarlas

comprometámonos firmemente a hacer los cambios que tengamos que hacer y que garanticen que el principio de igualdad ante la ley sea igual para todos por eso se llama principio de igualdad y que garanticen que los cargos públicos desarrollemos todas nuestras funciones en libertad sin coacciones esa es la cuestión principal un compromiso

y lo vuelvo a repetir pero en cualquier caso solicito el apoyo detoda la cámara para esto porque al final de lo que se trata es de garantizar
el principio de igualdad amaitzen joan de todos los ciudadanos ante la ley voy terminando y

puedan desarrollar todas sus funciones en libertad el compromiso del grupo socialista

ayer al mediodía participó usted en una conocida tertulia política de una cadena privada de televisión

muy suya por cierto se estaban refiriendo al tiempo transcurrido desde las elecciones generales del pasado mes de diciembre y dijo usted textualmente ha sido un circo mediático insoportable

no ha habido debate de verdad no ha habido debate de ideas pues bien señor maneiro yo no puedo estar más de acuerdo con usted en

y el consenso general es que en las cortes generales ha habido mucha actividad en estos cinco meses pero que no estaba orientada

representante del partido nacionalista vasco era una campaña electoral apócrifa o sea un enfrentamiento entre partidos más que

pseudo electoral pero con una apariencia de actividad parlamentaria normalizada qué ha pasado en madrid

non nata incapacidad para hablar y para pactar gestos y declaraciones de cara a la galería palabrerías sin contenido

pura postura o mejor dicho impostura lo que usted mismo califica

pues bien señor maneiro sabe usted cuál ha sido una de las pocas iniciativas y la más cacareada en esta cortísima legislatura apócrifa precisamente una muy parecida a la que nos trae usted hoy aquí

que casualmente le tiene a usted como candidato nos pide que participemos en otro circo

y de upyd con todo el respeto le digo

para su campaña volviendo a lo que dijo usted ayer señor maneiro

esperábamos tener un debate de ideas pero lo que hemos encontrado es una especie de apuesta por la escenificación en la que no voy a

en esta legislatura los aforamientos ya han sido objeto de debate y reflexión y curiosamente en estos momentos en los estertores de la legislatura

la discusión sobre esta figura por qué porque usted quiere transmitir la imagen a la opinión pública de que están en contra del aforamiento usted quiere transmitir que las propuestas de upyd

pese a la oposición del establishment y del bipartidismo a nosotros no nos parece que la preocupación

de los ciudadanos ante la ley porque para conjugar estas declaraciones en favor de la igualdad no se entiende que luego se conjuguen iniciativas que generan un tótum revolútum inusual que tienen toda la apariencia

señor maneiro que en españa en el reino de españa existe un nivel de aforamientos que no tiene parangón en otro estado democrático europeo más de un cuarto de millón de aforados en sus diferentes versiones

el aforamiento nació como una garantía de la libertad de expresión y de actuación política y de libertad en el ámbito de la administración de justicia pero es verdad que tras la transición se generalizó en exceso

el volumen de aforados es por eso que vemos necesario hacer una reflexión profunda

técnicamente solvente y bien asentada que pueda ser aceptada con un amplísimo consenso ya que estamos hablando de valores fundamentales en la construcción

que tenemos un debate constitucionalmente pendiente acerca de cuál es el nivel de aforamiento que corresponde y es por ello que mi grupo

y anuncio también la retirada de nuestra enmienda pero la formulación de las modificaciones legales por las que aboga el candidato maneiro ha de venir

de un estudio comparado de los modelos existentes en nuestro entorno analizando

como en el ámbito autonómico se ha de revisar todo este

de un tipo y de otro pero en un contexto de debate serio upyd y el señor maneiro se dicen herederos de las mejores tradiciones de la democracia liberal la ironía del destino hace

por esta corriente de pensamiento la figura ha perdurado en el tiempo para evitar que se pudiera instrumentalizar la justicia y se abrieran causas

por influencias presiones o motivaciones espurias qué significa el aforamiento ser aforado ha de ser una garantía democrática ha de ser una garantía democrática una protección no un privilegio como se ha dicho aquí las personas aforadas son igualmente juzgadas no quedan exentas de juicio la diferencia está en el órgano que dicta la resolución

un órgano unipersonal es un órgano colegiado

de una comunidad autónoma o bien el tribunal supremo el estado español se define como un estado social democrático y de derecho que propugna como valores superiores dentro del ordenamiento jurídico la igualdad la justicia

y el pluralismo político en el estado democrático la mejor garantía para impedir la instrumentalización de la política durante la detención o procesamiento penal

consiste en la máxima independencia de jueces y magistrados como también la separación de poderes del estado el problema del aforamiento es inseparable de la falta de independencia judicial lo que necesita el reino de españa es una justicia ágil e independiente en todas las instancias porque la justicia es lo que da una legitimidad última

el grado de politización de los tribunales es mayor a medida que se asciende en la jerarquía los jueces de instrucción

por el consejo general del poder judicial cuyos miembros se nombran a propuesta del congreso la politización siempre existió pero ha alcanzado su grado máximo desde la transición tras la última reforma del consejo general del poder judicial

porque no podemos hablar de democracia cuando la justicia se manipula y se usa

el aforamiento debe ser la herramienta para garantizar la independencia de las instituciones es la garantía para mantener la independencia tanto del poder legislativo

por la estrategia procesal y el tacticismo de algunos imputados o procesados o de sus respectivos partidos el problema es el mal uso de estas herramientas

junto con algunos mecanismos de intromisión de los poderes ejecutivo y legislativo en el poder judicial creo que el problema no es

ni el aforamiento sino el mal uso que ha llevado a la ciudadanía a asociar

parlamentarias con impunidad algo como se ha dicho antes que no es verdad algunos han optado por la fórmula más fácil suprimir

todos los aforados se puede no estar de acuerdo pregunto analicemos cuáles sí y cuáles no en ese sentido es cierto que no son lo mismo los cargos electos que los cargos de designación que desempeñan los altos cargos de la administración pública no es lo mismo ser aforado porque uno sea juez

ciudadana en el actual contexto social cunde el mensaje en este momento pero en el colectivo de aforados en sentido amplio policías jueces magistrados el colectivo de políticos es el más pequeño es un debate que tiene una profunda naturaleza jurídica y tenemos que ser

tenemos que centrar el debate en sus justos términos que en este caso no son solo políticos así se aprobó en esta cámara hace dos años donde se proponía reflexionar sobre el alcance que debe tener la figura del aforamiento

el orden de los factores señor maneiro sí altera el producto ustedes saben que el partido nacionalista vasco ha sido crítico con la figura del aforamiento

que puedan plantearse en todos los foros habidos y por haber de cara a plantear su reforma

de que es la propia política o somos quienes nos dedicamos a la política

con esfuerzos denodados de desprestigiar el propio ejercicio de la política carreras a ver quién antes quién más

con más intensidad y en este caso como si eliminar la institución del aforamiento

supusiera la piedra angular de la regeneración política definir así o sustentar una hipotética mejora del ejercicio de la política y por lo tanto también una regeneración política o modernización del ejercicio de la política en torno a la supresión del aforamiento

injusto y seguro que un profundo error

por un lado el aspecto jurídico la naturaleza jurídica de esta herramienta de esta institución que es debatible

y por otro lado su naturaleza de carácter política sobre el que cabe desde luego el debate de fondo su naturaleza política

su hipotético abuso el aforamiento

en una figura controvertida como ha recordado por encima el señor latxaga tiene su origen

en la que se trataba de proteger a los representantes políticos del poder del monarca que luego además coge el testigo también la propia

en la que ya se concreta más y en la que se convierte en algo más parecido al aforamiento

sobre el que debatimos hoy la realidad es que hoy día en pleno siglo veintiuno

que el aforamiento no se establece ni justifica

de la función pública que el propio ejercicio de ese cargo supone por lo tanto lo que pretende el aforamiento desde su punto de vista estrictamente jurídico es proteger a los miembros del gobierno y de los parlamentos frente a hipotéticas querellas de contenido

abusivo su fin por lo tanto el del aforamiento como datos objetivos es el de proteger la independencia

jurisdiccional frente a potenciales presiones externas

estamos hablando de un aspecto pura y estrictamente de carácter procesal de carácter procesal nadie por estar aforado

esto es algo que creo que sobre lo que podemos convenir todos siguiendo con ese análisis justo pretendidamente justo y sosegado

reconozco que también complicado en estos tiempo no por preelectorales sino por los tiempos en general habría que reconocer

que el aforamiento también supone a cambio de ser enjuiciados por un órgano superior al de instrucción de lugar de comisión del delito que los representantes políticos que disponen de esta prerrogativa

sufren una restricción el régimen de recursos contra la sentencia que pueda resultarles también perjudicial al propio aforado y ejemplos recientes también

y que el suplicatorio por lo tanto sobre el que deben pronunciarse las cámaras legislativas

otorga altavoz y publicidad a la posible denuncia pero no es menos cierto también

una hipotética denegación de suplicatorio por parte de la cámara legislativa

deberíamos convenir por tanto que el aforamiento no supone un privilegio personal sino que es una prerrogativa

coincidimos no estamos hablando de un privilegio sino que es una prerrogativa lo que sucede es que los tiempos cambian para algunas cosas a mejor

que las democracias como la nuestra se perfeccionan y que las instituciones

pueden modificarse hoy por lo tanto también podemos afirmar

institucional en españa contamos con un poder judicial independiente

y que ni las cortes generales ni los parlamentos autonómicos

una injerencia por lo tanto y como no estamos ni en la inglaterra medieval

y que nuestra democracia y nuestra división de poderes está perfeccionada podemos entender también que esta institución puede sufrir modificaciones

y esto conviene decirlo y recordarlo es más los políticos son minoría como aforados en españa si los cálculos y esto por cierto no lo digo como descargo de los políticos sino como un reflejo de una imagen fiel de la realidad porque si los datos generales

personas aforadas diez mil cargos institucionales aforados

corresponderían a fiscales jueces y magistrados otros cientos

y luego también habría políticos hay un debate que es de ámbito nacional sobre el aforamiento

porque también nos importa lo que pasa en el conjunto de españa obviamente pero hay una decisión que nos corresponde a nosotros

en euskadi está bien no pasa nada que instemos a las cortes generales a que hagan no sé qué cosas aunque todos tenemos representantes en cortes generales salvo el señor maneiro pero quizás

no tenga una representación cualificada pero

por lo tanto podríamos perfectamente haber impulsado a lo largo de esta legislatura pero seguro que a lo largo de la próxima lo vamos a hacer una modificación una reforma del

que elimine y que suprima la figura del aforamiento sin extenderme más no me he dejado la moción

vamos a apoyar el grupo parlamentario popular va a respaldar la enmienda de transacción acordada por los grupos parlamentarios que la firman

yo creo que ya lo saben pero voy a recordarlo que está aprobado

la constitución de una ponencia para estudiar la supresión del aforamiento con lo cual sería redundante sobre algo que ya han decidido en cortes generales que se vaya a hacer

esta ley que es del control de la actividad económica financiera de los partidos políticos

e impulsada mejor dicho por el gobierno del partido popular la legislatura anterior y apoyada por algún grupo parlamentario que ya habla de la eliminación del aforamiento eso son cosas que han cambiado con respecto a los últimos debates que hemos tenido en esta cámara

no va a provocar que no apoyemos esta enmienda de transacción y es que

constituye una ruptura del principio de igualdad ante la ley es erróneo porque es el propio tribunal constitucional en su sentencia de veintidós

que otorga al aforamiento pleno fundamento constitucional

del propio tribunal constitucional por lo tanto no rompe el principio de igualdad ante la ley otra cosa es que el legislador

la figura del aforamiento ha perdido vigencia eficacia y que puede dar lugar a abusos en su caso pero que es una figura constitucional con una naturaleza jurídica perfectamente entendible y debatible es inexcusable
indudable que también se está sujeta a su debate demagógico no es menos obvio gracias eskerrik asko sémper jauna

una cosa antes que nada los grupos que consideren que el aforamiento no debe suprimirse están a tiempo y pueden votar en contra de esta iniciativa

a favor de la supresión de los aforamientos porque en algún caso concreto he llegado a escuchar que es una figura necesaria con lo cual en fin nosotros lo que queremos es plantear

si ustedes no creen en estas ideas o no creen en la transaccional que hemos firmado

votar en contra es decir queremos que voten porque se lo creen porque efectivamente piensan que hay que suprimir la institución del aforamiento es lo que nosotros reivindicamos

tanto con el grupo socialista como incluso con el partido nacionalista vasco a pesar de que finalmente se ha quedado fuera porque yo evidentemente quiero que esta iniciativa salga adelante con el mayor número de votos posible y agradezco ya de antemano a todos los grupos que vayan a votar a favor por convencimiento porque creo que la transaccional firmada es lo suficientemente clara por cierto es una transaccional muy parecida a la que yo defendí en junio de dos mil catorce

setenta y cuatro votos en contra pero yo comprendo que ciertamente las cosas cambian y que ustedes han cambiado de posición y no pasa nada por eso y yo me alegro y efectivamente si ustedes finalmente van a votar a favor de esto pues lo celebramos ustedes todos ustedes han digamos

hay cosas que han cambiado en los últimos tiempos es cierto y han cambiado su posición al parecer en relación al aforamiento porque como decía esta transaccional

la misma que la que yo defendí en junio de dos mil catorce y que es muy sencillo de entender

esta figura nada más y nada menos por las razones que he expuesto en mi primera intervención y que creo que están perfectamente explicadas y justificadas el señor agirrezabala decía que miramos a madrid es que tenemos que mirar a madrid

leyes incluida evidentemente la reforma de la constitución que no dependen de nosotros sino que dependen del congreso de los diputados y por lo tanto hay que instar a las cortes a que inicien esa reforma es por eso por lo que nosotros instamos a las cortes por lo demás

muy difícil justificación que en este momento eh bildu se vaya a quedar solo absteniéndose votando o absteniéndose en relación a esta transaccional que van a apoyar todos los demás grupos pero en fin allá cada cual decía la señora gallastegui que impedir la impunidad

a los aforados y estoy básicamente de acuerdo lo que pasa es que

puede traer como consecuencia de que haya impunidad y que determinadas personas tengan un juicio diferente del que tendrían

por lo tanto fueran ciudadanos normales y corrientes como todos los demás

esta institución porque como decía al principio el tribunal supremo o los tribunales superiores de justicia además del tribunal constitucional son tribunales que están politizados

son elegidos por los propios partidos políticos por lo tanto si después se les juzga a esos miembros de esos partidos políticos es evidente que se puede sospechar

ciudadano decía la señora gallastegui que planteemos todas estas reformas para que se den los pasos apropiados

desde el año dos mil siete casi siempre nos quedábamos solos en este tipo de iniciativas ahora las cosas están cambiando e incluso estamos consiguiendo que este tipo de iniciativas salga

es el postureo las declaraciones en televisión las ruedas de prensa que no sirven para nada todo ese tipo de juego político que hemos padecido durante los últimos cinco meses y que yo llevo criticando durante semanas

no es que un parlamentario traiga a una institución una propuesta concreta para implementar las reformas legales necesarias para

esto no es un circo mediático esto es defender unas ideas en las que uno cree

lo he defendido en varias ocasiones ahora ha coincidido que hay elecciones pero igualmente defendí cosa parecida

es el de otros partidos políticos quizás en otros foros pero evidentemente no el nuestro

el problema haya sido el mal uso o el abuso del aforamiento yo creo que es la propia figura del aforamiento la que hay que suprimir simplemente por su propia existencia y por que permite que haya determinados ciudadanos que reciben un trato distinto

no he hablado solamente de políticos no he hablado solamente de cargos públicos he expuesto una larga lista

porque esta institución afecta a otras muchas personas y nosotros queremos suprimir en todo caso todos los aforamientos por lo tanto no hemos hecho ningún tipo de demagogia tampoco he dicho yo que la supresión de los aforamientos sea la piedra angular de la regeneración política señor semper yo no he dicho eso y si lo hubiera dicho usted podría haber dicho que eso es inexacto e injusto pero yo no he dicho eso esta es una de esas medidas que hay que llevar junto con otras muchas esto no va a solucionar todos los problemas de españa pero creo que es una de esas medidas que ciertamente es indispensable llevar a cabo
como amaitu mesedez con permiso presidenta como

no quiero recordar las cosas que se me dijeron en esta misma cámara hace dos años por parte de algunos de ustedes

o cuando se criticó la posición de upyd lo importante es que ahora estamos de acuerdo

señor maneiro no ha andado muy fino en su segunda en su turno

porque primero no ha acertado en lo que son los números todos votamos en contra de su propuesta del doce de junio de dos mil catorce eso no es cierto mírese el acta de sesiones de entonces los que votaron en contra fueron cincuenta y tres eh bildu no votó en contra

de la propuesta de la erdibidekoa

ustedes upyd el partido popular y el partido socialista nos dan mucho miedo

lo he dicho en mi primera intervención pero desde luego lo que sí tenemos muy claro cuál es nuestro posicionamiento cuál es nuestra posición con respecto al aforamiento

gallastegui bueno yo le tengo que reconocer mire yo no soy jurista y entonces tengo que beber de algunas fuentes

es la wikipedia y es muy posible que el representante de su partido en el senado pues

el señor maneiro también bebe de la misma fuente no hay más que mirar la interpelación que le hizo el señor maneiro al señor erkoreka está cogido de la wikipedia gran parte de ello pero bueno como

pero bueno vamos a ir a los tres puntos que usted planteaba aquí encima de la mesa primer tema es que bildu me decía que con respecto al debate que tuvimos hace dos años pues bueno que hemos hecho un recorrido

el recorrido lo han hecho ustedes no tiene más que ver lo que usted propuso aquí

que considera procedente abrir un proceso de examen y reflexión y hoy nos ha venido efectivamente que están con una posición muchísimo más clara pero es que euskal herria bildu lo que hoy ha planteado es lo mismo que planteó

hace dos años parlamento vasco insta a realizar las reformas legales necesarias para que todos los ciudadanos y ciudadanas incluidos los cargos públicos reciban el mismo trato ante la administración de eso mismo hemos defendido hoy también es cierto

que estuvimos hablando del tema de la excepcionalidad y me ratifico

se encargará de ello no obstante y me ratifico en lo que dijimos

arbitrarias por opiniones o declaraciones políticas de cargos públicos dos años después por ello el parlamento vasco

al gobierno español a impulsar un cauce legislativo para suspender los tribunales normativas

y la ley de partidos ese tema también lo trajimos pero hoy lo hemos querido separar porque más despacio en otro momento tercera cuestión

me decía que eh bildu a ver qué vamos a votar en el congreso en el senado cuando estemos porque estaremos no sé cómo duda de esto

no sé cómo duda de esto porque lo que sí tenemos claro es que la postura que hemos mantenido y que mantenemos en este parlamento vasco la vamos a mantener también

en el senado ahí que no le quepa ninguna duda tercer tema

yo creo que usted el tema de la injerencia lo mira solamente desde un punto de vista

jurídico y desde el punto de vista jurídico hay dos

que es que la modificación de los estatutos de autonomía está regulada por los propios estatutos de autonomía primera cuestión y segunda cuestión una modificación de la constitución española supondría tener que modificar algunos de los artículos del capítulo tercero del título ocho

desde el punto de vista jurídico que supone una injerencia importante una injerencia grave y yo lo he enfocado desde otro punto de vista

político y desde el punto de vista político y aquí sí que voy a tirar del diario de sesiones del senado le revelo mi segunda fuente que

desde luego compartimos totalmente en cataluña hemos empezado un proceso participativo constituyente en el que los ciudadanos serán

constitucional que en su día se va a someter a referéndum del pueblo soberano y creo que ya sería hora de que

sea españa o cataluña el soberano solo es uno el pueblo nosotros

bien buenos días de nuevo señorías para usted la perra gorda señor maneiro yo no tengo ningún problema en aceptarle que es usted el promotor

es agradecer a los grupos que hayan mostrado su apoyo a esta enmienda transaccional que yo creo que mejora sustancialmente

lo que tenemos intención de hacer por lo menos y en ese sentido me parece

muy importante señor agirrezabala tenía clarísimo cuál era la fuente es decir

la fuente de sus intervenciones porque usted ha fusilado directamente el diario de sesiones del senado cuando hace referencia a la injerencia y empiezo por el final porque ha traducido directamente y exactamente

parlamentario vasco en el senado pero literalmente incluidas las comas y las pausas y para

porque nosotros ya estamos diciendo en el apartado tercero de nuestra enmienda transaccional que la reforma y el desaforamiento en su caso de los parlamentarios vascos y en su caso de lehendakari y de los miembros del gobierno se va a residenciar en modificación del estatuto de autonomía por lo tanto

no veo qué injerencia lee usted en esta enmienda porque lo que habla el señor cazalis era de otra cuestión y usted lo que ha hecho ha sido leerse lo que ha escrito transcribirlo pero

planteamiento de cómo se va a hacer aquí esta modificación

es decir ya se decidirá y lo que estamos diciendo además es que se tiene que decidir con el máximo consenso posible

por esa vía por la vía de reforma constitucional y menos a la hora de establecer cuáles van a ser los criterios de desaforamiento o de establecer garantías para los parlamentarios autonómicos

le he dicho qué es lo que va a hacer usted con los parlamentarios vascos del grupo bildu en españa

a mí eso me importa un jamón yo quiero que los parlamentarios vascos en euskadi estén desaforados pero los parlamentarios vascos en españa que pertenecen a mi grupo

eso es de lo que estábamos hablando en definitiva y para resumir

en esta cuestión es manifestarles el agradecimiento por el apoyo a la enmienda transaccional que obviamente

porque el proponente es el señor maneiro y entiendo que por cortesía parlamentaria quien debe intentar concitar los acuerdos es él

que yo no tengo ningún problema para transaccionar o intentar transaccionar con usted cualquier cosa pero entiendo que a quien le corresponde iniciar los caminos para poder llegar a un acuerdo

oiga acuerde usted conmigo y vamos a dejar al proponente fuera en definitiva yo creo que hemos dado señorías un paso adelante yo creo que hay una manifestación

le reitero el compromiso del grupo socialista para buscar

en las que estemos los socialistas vascos y los socialistas españoles

en fin modificar esto que igual constitucionalmente por sentencia del tribunal constitucional no vulnera el principio de igualdad efectivamente pero lo cierto es que la percepción es que no es necesario que determinadas personas simplemente por el hecho

que no quiere decir que estén más protegidas exactamente gracias eskerrik asko gallastegui andrea

clara la postura de euzko abertzaleak de nuestro grupo

de aforamiento vigente a día de hoy en el estado español

ni con la cantidad de personas afectadas se trata de un tema de gran importancia

tenemos que llegar a un acuerdo tenemos que trabajar para llegar a ese acuerdo de una forma consensuada y coordinada

pero también quiero decir que en los países democráticos y aquí también

un aforamiento desvinculado del ejercicio de las funciones públicas porque entonces sí estaríamos hablando de un verdadero privilegio

la preocupación por algunos de los aspectos de la transaccional se insta a las cortes generales de hacer una serie de cuestiones

sí creemos que en algunos de los aspectos sobre todo en la primera redacción de la transaccional

en la autonomía y a su vez en esta transaccional se insta al gobierno vasco

promover las reformas pertinentes y demás cuando es este parlamento quien tiene que abordar cualquier reforma estatutaria está residenciada en este parlamento además el mandato

esas reformas necesarias para la supresión o la eliminación parcial de los aforamientos en ese sentido estaríamos en la onda que plantea

su segundo punto cuando habla precisamente de que habría que constituir una ponencia que proponga las modificaciones

y creemos que es un poco lo que habría que hacer

poner el carro antes que los bueyes en ese caso los bueyes antes que el carro

se lo he dicho antes de manera privada que se parte de un apriorismo

que no es bueno porque ya parte de la idea de que se han de suprimir

con esa idea pero pensamos que no hay que

a una sentencia previa a lo que la ponencia tuviese que decir

creo que usted entra en una pequeña contradicción porque habla

de eliminar los aforamientos y seguidamente dice que hay que garantizar la labor política de los representantes públicos en libertad creo que se pone un poquito

es decir creo que de alguna manera vamos a dejar a la ponencia

que se ponga a ello para que de alguna manera juzgue cuál es la vía correcta sin

euskal herria bildu y volvemos a reiterar nuestra postura como le he dicho antes al señor maneiro

un debate pendiente pero un debate en serio y que las modificaciones que se vayan a propugnar

con los modelos del entorno y tanto a nivel estatal como a nivel autonómico creemos que esa es la manera seria de abordar un debate de estas

abroncándonos al resto de parlamentarios lo cual no es novedad pero no deja de ser reseñable cuando usted decía bueno si no les gusta pueden votar que no

libremente o por lo menos decir que podemos votar lo que nos dé la gana en segundo lugar

que le tengo que eso políticamente es irrelevante pero lo digo porque es así a veces usted hace unos empeños titánicospara no concitar acuerdos a veces usted

para que discrepemos con usted usted ha salido a esta tribuna a abroncarnos a los demás porque antes votamos no sé qué y ahora votamos no sé cuántos porque hemos cambiado porque ya no décimos lo mismo etcétera mire yo entiendo que esto puede ser puede sorprenderle a alguien que entiende el mundo y la política en blancos y negros inamovibles y que cuando él se

le parecen poco más o menos que herejes de la política pero es que esto es la realidad de la vida

las reflexiones se producen la política evoluciona y tenemos libertad

injustamente reconocido en esta cámara y por la sociedad vasca y los demás no tenemos esa suerte pero

ha habido cambios ha habido reflexiones que van madurando y ha habido cambios

que usted no me ha querido escuchar pero se lo repito una ley aprobadas en cortes generales a instancias del gobierno del partido popular que es para no equivocarme lo digo de la actividad económica financiera de los partidos políticos aprobada en la pasada legislatura con un gobierno del partido popular contempla la supresión del aforamiento

esto ya está aprobado en el congreso de los diputados es que el senado ha aprobado

del partido popular en la que pide la constitución de una ponencia estudiar la eliminación del aforamiento esto ha sucedido también y ustedes aquí insisto a pesar de esto vamos a apoyar la enmienda de transacción siguen insistiendo e instando a cortes generales a que aborde no sé qué reforma bueno

también está encaminado una reforma ya aprobada en la asamblea de la comunidad de madrid en este sentido para eliminar entre otras cosas

el mandato de los gobernantes y porque hay una realidad que tampoco ustedes

pero que tampoco ustedes creo que han identificado o han reconocido y es que sin necesidad de reformar la constitución podríamos reducir los aforamientos en españa de los diez mil actuales en torno de diez mil

taxativamente la constitución española como personas aforadas esto yo creo que

que quizás no es lo que interesa en estos momentos me hago cargo

para terminar insisto lamento mucho que ninguno de ustedes haya dicho con absoluta contundencia

es una cuestión procesal exclusivamente de contenido procesal porque nadie por el hecho de estar aforado está

no es cierto decir y es un error que además tiene consecuencias negativas para el ejercicio de la política decir que el aforamiento es un privilegio

de carácter procesal porque la pregunta que también cabe hacerse entonces a quien dice que es un privilegio sería es que no se confía en la profesionalidad o en la independencia por ejemplo de los órganos colegiados en este caso de un tribunal supremo

que serían los que tienen que juzgar en su caso a diputados y senadores o a parlamentarios de esta cámara

a los que estamos en todo caso o en última instancia sujetos en el supuesto de ser denunciados

de que este parlamento o el congreso o el senado concedieran el suplicatorio y para terminar

que los más nacionalistas se encargan siempre de hablar de madrid de la constitución y de españa y no se encargan de hablar de lo que podemos hacer en esta cámara que es mucho mire señor latxaga usted hacía referencia a la ponencia del autogobierno bien traído

de reformas de estas características cero sabe usted qué ha protagonizado sabe usted que ha protagonizado a instancias de los nacionalistas señor maneiro sí que usted ha sido el pionero en todo sabe usted la materia fundamental impulsada por los nacionalistas el manido nuevo estatus sabe que en esta cámara podíamos haber emprendido sin ningún problema si hubiera habido voluntad una reforma del estatuto de autonomía para acabar con la figura del aforamiento lo podemos hacer ya pero no interesa los debate que interesan a los nacionalistas son otros los que suceden en madrid

pero creo que como representante de los vascos y con capacidad legislativa que es la que nos han otorgado los vascos y por lo que estamos aquí podemos emprender reformas sin esperar a nada ni a nadie

ni nada y si los parlamentarios de esta cámara creemos que la figura del aforamiento

y hacerlo lo que sucede es que las prioridades me temo en cualquier caso y fundamentalmente para ustedes en cuanto a reforma del estatuto son otras
pero de esto seguro que hablamos en la próxima legislatura muchas gracias eskerrik asko

consejeras consejero señoras y señores parlamentarios buenos días

como consecuencia de la interpelación presentada por este parlamentario a la señora consejera de desarrollo económico y competitividad la señora tapia presentamos esta moción sobre la participación del gobierno vasco en los procesos abiertos sobre

de las subvenciones y ayudas concedidas y como no vemos al gobierno convencido en remangarse en este asunto pues es lógico pues que hagamos

con esta moción queremos ayudar al gobierno vasco ante el panorama que se presenta en procedimientos penales mercantiles las propias actuaciones del tribunal de cuentas públicas en relación

a las asociaciones que impulsaban el fracasado proyecto empresarial de hiriko y queremos ayudarle

en la labor de recuperar el total de ayudas públicas concedidas a esa apuesta fallida el caso hiriko un caso

ahí están las primeras actuaciones judiciales fiscales las primeras informaciones a través de los medios de comunicación

con su comisión de investigación después escritos actuaciones ante el juzgado por parte de la fiscalía tribunales mercantiles y penales tribunales de cuentas acreedores denunciantes sin ir más lejos la propia fundación

solicitudes de devolución por actuación de los servicios jurídicos de distintas instituciones y recordemos la abogacía del estado en relación con

subvenciones concedidas por el ministerio de ciencia tecnología e innovación en su momento

en relación con esta cuestión trabajando para solicitar los reintegros oportunos peticiones como la calificación de

otras peticiones fiscales en relación con las responsabilidades personales la calificación esa de quiebra fraudulenta como elemento central en la actualidad y la solicitudes de reintegro pues como cuestión económica

y ahí están sus actuaciones por hacer un poco de historia reciente recordemos las conclusiones de la comisión de investigación llevada a cabo en esta misma legislatura en esta cámara

se ha financiado prácticamente en su totalidad con ayudas públicas del gobierno central y del gobierno vasco así como una menor cuantía de la diputación foral de álava

bien perdidas definitivamente o bien en manos de empresas privadas que se puedan encontrar con

adquisición y utilización las relaciones económicas entre las asociaciones afypaida denokinn etcétera el instituto tecnológico de massachusetts

consorciadas y subcontratadas suponen un complicado enjambre de operaciones al que hay que estar especialmente fundamentadas en fondos públicos

valorar y calificar y todo eso se ha producido desde entonces el gobierno vasco careció de una falta de visión estratégica al no haber apreciado los riesgos en relación con la necesidad de homologación del proyecto hiriko se habla de la responsabilidad en relación con en aras el rigor y a la información especializada y

eso se ha ido produciendo desde precisamente desde que votamos y desde que aprobamos ese informe en la comisión de investigación

ekintzaile ha tenido una responsabilidad in vigilando en relación con el proyecto como todos ustedes conocen en cualquier caso se pasaba las recomendaciones

las actuaciones fueron instar al tribunal de cuentas del estado a que realice un informe de fiscalización de las distintas ayudas subvenciones avales prestamos hablábamos en aquel momento de epsilon e hiriko

proyecto hiriko a las asociaciones afypaida y denokinn así como el resto de empresas relacionadas con el citado proyecto había recibido del conjunto de las administraciones públicas y eso se ha producido y no solamente se ha producido

a entender que la virtualidad de esas recomendaciones se

ver que se ha trabajado y que podemos trabajar también sobre esas bases y que el gobierno como otras instituciones también debe de hacerlo también en aquellas recomendaciones estaba el tribunal de cuentas

cumplimentó el parlamento vasco insta al gobierno vasco ha que clarifique en aras a la eficacia a la transparencia de seguridad jurídica en lo relativo al uso y control de los fondos públicos que se destina a asociaciones sin ánimo de lucro bueno ahí está algunos pasos se han podido dar pero

a que formalice la petición de la devolución de las ayudas y subvenciones concedidas a afypaida y sobre eso volvemos hablar hoy también por otro lado

ocho procedimientos de reintegro por las ayudas concedidas por las tres administraciones

gobierno central y diputación foral de álava se trata de que quienes hayan

se hagan cargo del perjuicio económico producido casi nada en relación con lo que puede devenir si los procedimientos siguen por todo ello el gobierno

nosotros entendemos que debe el gobierno vasco de actuar en relación con esa devolución con ese reintegro de las cantidades aportadas también

hacía referencia pero quiero también apoyarme en eso como significa el informe del tribunal de cuentas de enero

en lo relativo a los apoyos procedentes de la comunidad autónoma del país vasco se decían cuestiones definitivas en relación con las subvenciones concedidas las subvenciones concedidas por la administración de la comunidad autónoma vasca y sus sociedades mercantiles dependientes entre

se concretaban las cantidades y se decía que en las convocatorias dos mil diez dos mil once dos mil doce del programa autonómico etorgai en la evaluación de la propuesta presentada por el consorcio y por parte de los órganos gestores ofrece

se supera el porcentaje de subvención máxima previsto por los artículos de las normas reguladoras cabe hacer extensivas las deficiencias señaladas antes había ese informe del tribunal de cuentas

al proyecto hiriko y se decía que se requiere

tal y como posibilitaba esa orden además los gastos de personal cuestión importante que ya tuvimos oportunidad

en declaraciones de los propios beneficiarios sin que se acreditasen convenientemente su realidad sin que conste actuación del órgano gestor

también dice es decir enlas consideraciones del tribunal de cuentas que

ese mismo programa siete de los diez integrantes se desarrollaban por consorcios empresariales equilibrados ello agravado por la ausencia

sobre la solvencia económica de las entidades participantes para ejecutar los proyectos no se procedió en relación con empresas ahí se detallan empresas que participaban en el proyecto no se

gastos no aparecen debidamente justificados y se habla de un buen número de ellos en las convocatorias dos mil once de las ayudas etorgai afypaida no constituyó las garantías recogidas

subvenciones gastos adecuadamente justificados no se ha documentado

de sus obligaciones tributarias ante la ausencia de acreditación del incumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social es decir estamos hablando de un cúmulo de irregularidades

pone de manifiesto también el tribunal de cuentas y que le hace actuar a él y a otras

instancias jurídicas fundamentalmente en la

ni afypaida ni basque robot wheels scincuenta una de las empresas

correspondiente además no consta la presentación de justificación del cumplimiento global del proyecto es decir afypaida y la empresa recibieron miles de euros cada una de ellas por subvenciones de acompañamiento del programa ekintzaile sin que de la documentación obrante

estas ayudas por otra parte los expedientes no incluían toda la documentación justificada señalada y adicionalmente gastos de viajes

su relación con el proyecto además gastos por miles de euros realizados dentro del periodo otorgado por la comisión

es decir un sinfín de irregularidades en relación con esta cuestión señorías algo hay que hacer

presentado una moción yo anuncio que voy a votar a favor de la moción la moción

parece bien no les parece correcto bien

sencilla luego hay alguna de las enmiendas de totalidad que también si no se

dice el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que exija en las causas

acusación particular la devolución del importe completo de las subvenciones y ayudas otorgadas a las empresas y asociaciones promotoras del fallido proyecto

entiendo muy interesantes las consideraciones que hacen en sus mociones los tres grupos parlamentarios

vuelvo a decir si mi moción queda rechazada yo apoyaré yo entiendo que hay que buscar

es necesario que el gobierno vasco no se quede parado en este tema

recurra a todo lo

pues para hacer lo que otras administraciones han hecho vuelvo a recordar el gobierno de españa ahí están los escritos

la diputación foral de álava ayer mismo el propio diputado general en relación con estas cuestiones y con las deudas que tienen pendientes van a emprender acciones el tribunal de cuentas con sus ocho expedientes de reintegro de subvenciones pues ahí está o la abogacía del estado

con sus escritos en relación con alguna otra cuestión que tiene que ver con la calificación

que están sobre la mesa qué tiene que hacer el gobierno vasco

tiene que hacer lo que nuestra moción indica y lo que también indican el resto de enmiendas de totalidad

aprueben la moción que se votará en primer lugar muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna

vuelve otra vez el caso hiriko a este salón de plenos es ya un clásico de la legislatura junto con otros episodios más o menos que todos tenemos en mente y la verdad es que a estas alturas las peripecias finales de este insensato proyecto pseudo empresarial de fabricar un coche eléctrico urbano revolucionario made in euskadi no debiera ocupar ni un minuto de la atención de esta cámara

que estableció las responsabilidades políticas y también los fallos procedimentales y de control en lo que la administración vasca incurrió en los casos hiriko y epsilon y ahora es el momento

y también las patrimoniales que puedan corresponder a las personas que pusieron en marcha y administraron ese tinglado porque hiriko no es un proyecto empresarial fallido como cariñosamente lo suele calificar la señora tapia no hay más que ver las calificaciones de la fiscalía en las causas que se siguen en los tribunales que son bastante menos suaves en sus expresiones tanto en un juzgado de lo mercantil

como sobre todo en la causa penal abierta malversación falsedad documental y apropiación indebida esos son los cargos que el fiscal atribuye a seis antiguos responsables de hiriko

de los dieciocho de ayudas públicas que fundieron porque lo original de este proyecto empresarial entre comillas

epsilon es que sus promotores beneficiarios no incurrían sorprendentemente en riesgo patrimonial ni propio

sino que todo eso iba por cuenta de las administraciones públicas esto es conocido y como he señalado antes no debiera ocuparnos

el problema es que si el gobierno del pnv hubiera actuado más activamente y con diligencia en la protección de los intereses públicos comprometidos en estos episodios quizás las cosas

recordemos brevemente el grupo nacionalista no apoyó la creación de la comisión de investigación parlamentaria sobre los casos hiriko y epsilon

y recomendaciones aprobadas no se sabe bien si porque ambos proyectos contaban con las bendiciones del pnv

o por ambas cosas juntas el caso es que si el gobierno vasco está personado como es ahora como acusación particular en el caso hiriko ha sido porque desde esta cámara

y le instamos porque no veíamos ni ganas ni disposición en ese sentido ya sabemos además que las ayudas concedidas por el gobierno vasco a hiriko son una mínima parte

dos coma dos millónes de euros frente a los alrededor de dieciséis logrados del gobierno central

se gastaron en los desarrollos tecnológicos e industriales para los que fueron otorgados porque hay una diferencia entre una y otra llegada de dinero a diferencia de las subvenciones arrancadas políticamente por el pnv de los presupuestos generales del estado para los promotores de hiriko las ayudas del gobierno vasco se dieron de forma competitiva

no pocas críticas por cierto desde medios de comunicación vinculados al pnv por no entregarse con entusiasmo a este empeño revolucionario afortunadamente no lo hizo y la razón es que no veía una base empresarial solida e industrial en la iniciativa de unos señores que por cierto

y que además no ponían ni un euro de su cartera gracias probablemente a esa prudencia y ese rigor del anterior gobierno

como también pasó con epsilon el perjuicio patrimonial que ha podido sufrir la administración vasca

pero eso no significa que el gobierno vasco tenga que ponerse de perfil ante este fiasco es su deber estar en los procesos judiciales activamente como parte también perjudicada y además es su obligación irrenunciable intentar recuperar el máximo de fondos públicos propios

eso parece algo tan elemental y tan de sentido común que no debiéramos perder ni un segundo en proclamarlo aquí pero parece que sí hay que hacerlo nuevamente

por parte de este gobierno en este punto como sucedió la semana pasada con el debate sobre la tibieza

nos entra una cierta sospecha de que esa actitud tenga mucho que ver con la afiliación política de la mayoría de los encausados y con el respaldo también político que recibió ese revolucionario coche eléctrico vasco un negocio que por cierto no supo ver ninguna otra gran compañía automovilística es por eso que mi grupo va a apoyar un nuevo llamamiento

del que se aprobó aquí hace catorce meses al gobierno para que cumpla su obligación

y se esfuerce de verdad en recuperar los fondos públicos que se acredite judicialmente que fueron utilizados

muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

jaurlaritzak iruzur horren aurrean egin beharrezkoaz jardungo gara durante estas últimas semanas hemos ido conociendo cómo la asociación

también se valió de sus influencias políticas recordemos que fue creada por personas que hoy ocupan altos cargos de representación política en el pnv en las instituciones gracias a sus influencias accedieron a cantidades importantes de dinero público

en su declaración judicial porque no tenían porqué justificar nada recordemos que el señor macías era

y máximo responsable de denokkin entre otras funciones mucho menos claras

operandi de esta trama de corrupción que está llamada a ser junto con de miguel una trama que acabe por arrastrar a gente que fue y es

el otro día en una entrevista para un medio me preguntaban si consideraba que el gobierno está respondiendo bien ante los casos de presunta corrupción que han aparecido mi respuesta fue la siguiente a mi parecer el gobierno no es que esté respondiendo bien o mal sino que no ha hecho nada que defenderse y defender a los suyos por los suyos me refiero a toda esa gente del pnv

lo vimos hace tiempo con los abrazos y aplausos a su salida del parlamento a alfredo de miguel y lo vemos hoy cuando personas que participaron en la trama de hiriko

de los extractores de dinero público o desde las figuras públicas que les permitieron acometer sus fechorías fueron premiadas con cargos de designación política

gertatuko da creo que esto es cuestión de tiempo algún día seguramente más pronto que tarde los jueces o fiscales encontrarán cómo entrarles y ese día

con el estado español con el partido popular y su maquinaria de corrupción

las puertas giratorias etcétera no son actuaciones aisladas de determinadas personas sino que es la manera en la que se refuerza

en el desmantelamiento del estado de bienestar y en el robo sistemático de dinero público cometen sus tropelías a través de contratos o relaciones preferentes con determinados partidos políticos

ni mucho menos de lo que hablamos hoy es de una trama de intereses relacionados con el partido nacionalista vasco

a aquellos que cogieron el dinero y corrieron y la razón es simple son personas del partido nacionalista y que hacían lo que seguramente entendían que es algo normal hausnarketa horretatik dator gure osoko zuzenketa ez baduzue aukera izan irakurtzeko

el parlamento insta al gobierno a que manifieste

y celeridad el código ético al contrario de como ha actuado hasta ahora cuarto punto el parlamento insta al gobierno a que elimine la posibilidad de formalizar relaciones de contrato con la administración pública para toda persona o empresas que hayan sido encausadas por cualquier delito relacionada con la corrupción

le insta a que elimine definitivamente la posibilidad de formalizar relaciones de contrato con la administración pública vasca para las personas y empresas que han sido juzgadas y condenadas

en relación al punto sobre el código ético creo que todos y todas las aquí presentes asumimos que la actuación del gobierno en la aplicación tiene de todo menos ética la dejadez es total las veces que se ha aplicado ha sido porque el parlamento se lo ha exigido y además a sabiendas que no iban a hacer absolutamente nada

pero aquí no pasa absolutamente nada que los tribunales de cuentas dicen que es irregular no pasa nada que hay quiebra culpable no pasa absolutamente que se investiga a los promotores del proyecto hiriko por delitos graves no pasa absolutamente nada

a que aquellas personas o empresas que se hayan visito envueltas

y si finalmente son condenadas no puedan volver a acceder a contrataciones con la administración pública no podemos taparnos los ojos y asumir como si fuese un acto sobrevenido que aquellas personas que desde sus puestos en la administración pública acaban actuando corruptamente favoreciendo los intereses de terceros es simplemente porque han tenido

que les imponía a conceder contratos o convenios a determinadas empresas a cambio de nada

de capitalismo de amiguetes en el que algunos quieren privatizar todo para regalárselo a sus amigos o bien les conceden todas las contrataciones públicas siempre a las mismas empresas

en perjuicio de las condiciones laborales de los y las trabajadoras y de la ciudadanía y repito en este mundo de capitalismo de amiguetes y de tráfico de influencias tanta culpa tiene aquellos que se corrompen como los que corrompen hoy es el día

enfangadas en las tramas de corrupción de hecho lo son por delitos menores por lo que seguir corrompiendo les sale absolutamente a saldo neurri bat proposatzen dizuet

baina ustelei mugarik jartzen ez badiegu nekez bukatuko dugu ustelkeriarekin si no ponemos límites a los corruptores difícil será acabar con la corrupción si no ponemos límites a aquellos que permiten sobrecostes en las obras del tav por encima de lo razonable

acabaron en sobres y así han sido juzgadas y condenadas algunas de las empresas por el ave en españa empresas que hoy están trabajando en el tav

con que se pueda presentar proyectos sin tener que dar explicaciones sobre las facturas que justificarían la subvención casos como el de hiriko se volverán a repetir sino acabamos con los corruptores aquellos que hoy que se creen que las instituciones son suyas

pongamos soluciones y no buenas palabras al cáncer que pudre la gestión pública pongamos soluciones al grave problema de la corrupción que aquí también sufrimos

sí gracias presidenta el grupo popular nos propone que instemos al parlamento al gobierno vasco a que exija

la devolución del importe completo de las subvenciones ayudas otorgadas a las empresas asociaciones promotoras del fallido proyecto más allá de que nosotros hayamos presentado una enmienda de totalidad que entendemos

a la original aunque quizás algo más completa votaremos también a favor de la moción del grupo popular y esperamos que de algún modo u otro algunas

adelante no vaya a ser que porque no haya finalmente enmienda transaccional no salga ninguna por lo tanto sería interesante

se recoge en la iniciativa original o que otros grupos podemos plantear salga finalmente adelante con los votos quizás en contra únicos votos del grupo

se resiste a hacer todo lo que se debería hacer para aclarar esta cuestión y recuperar el dinero público que supuestamente hemos perdido la fiscalía de álava ha solicitado al juzgado de lo mercantil la declaración de quiebra fraudulenta de la sociedad afypaida promotora del

y solicita para sus principales promotores diez años de inhabilitación y a las empresas participantes que devuelvan quince coma siete millónes de euros recibidos como subvenciones por parte de diferentes instituciones públicas en la misma línea se inscribe también la postura de la abogada del estado

importantes subvenciones que otorgó el gobierno de españa a afypaida a instancias y a petición

también la administración concursal solicita la declaración de quiebra fraudulenta el gobierno vasco ciertamente no ha querido actuar y ha seguido manteniendo que se trato sin más de un fracaso empresarial tanto la comisión de investigación que se desarrolló en este parlamento

dejan claro el enorme fiasco del proyecto hiriko fiasco semejante al de epsilon el otro gran sueño automovilístico del partido nacionalista vasco que solo sirvió para el enriquecimiento de determinados amigos o compañeros del partido nacionalista vasco ambos proyectos

más de sesenta millónes de euros las apreciaciones del fiscal

falta de rigor en el modelo de negocio actuación descuidada

empresa cuyo único fin era el enriquecimiento de los administradores y todo ello provocó

de los fondos públicos podemos recordar que el principal pagador de esas ayudas fue el estado el gobierno de españa pero que lo fue a instancias del partido nacionalista vasco en aquellas negociaciones presupuestarias absolutamente vergonzosas con el partido socialista del señor

que las instituciones vascas concedieron

juicio del tribunal vasco de cuentas se dieron sin garantías creo que son razones de peso como para que podamos apoyar la moción planteada por el señor

ante la corrupción o ante la mala gestión creo que todos nosotros debemos ser claros y contundentes también el gobierno vasco y también el partido que sustenta a este gobierno vasco también el partido nacionalista vasco podemos recordar que el partido nacionalista vasco votó en contra de la creación de la comisión de investigación que el partido nacionalista vasco votó en contra de las conclusiones de esa comisión de investigación quedándose en la más absoluta soledad podemos recordar también que el gobierno vasco no quiso mover nunca un dedo y solo lo movió cuando fue instado este parlamento podemos recordar que el gobierno vasco solo se personó en la causa cuando este parlamento se lo pidió insistentemente y podemos recordar que este

todo el dinero público entregado a este proyecto absolutamente fracasado no es un proyecto empresarial fallido

que eso y tampoco creo que sea un proyecto insensato creo que al margen de calificativos es sobre todo un proyecto que nos ha costado a todos los vascos millónes de euros esto es lo importante no ha servido para nada y nos ha costado millónes de euros y yo creo que lo esencial de todo esto

que nos ha costado millónes de euros y que no ha servido para nada detrás de este proyecto están destacados amigos compañeros del partido nacionalista vasco y de ahí que el grupo nacionalistas vascos y este gobierno intenten que este asunto no se aclare

que detrás de este proyecto absolutamente fracasado están destacados militantes del partido nacionalista vasco ante esto hace falta

y contundencia por eso votaremos a favor de la moción del grupo popular y de las enmiendas que básicamente plantean cosas parecidas en relación a esta cuestión gracias

esanguratsuak zirenak txosten horiek pikutara bidaltzen zituzten ondorio horietako askok pero no voy a retomar aquel debate

como les he dicho las conclusiones de aquella comisión trasladaban al gobierno varias recomendaciones y todos los grupos en un momento u otro han preguntado al gobierno sobre el cumplimiento de las mismas y el gobierno una y otra vez ha contestado que las está aplicando punto

salvo preguntas sobre este asunto hasta marzo del dos mil quince a punto de comenzar la campaña electoral de las municipales

unas elecciones son un gozoso campo para intentar resucitar lo que ya estaba finiquitado al menos en lo que al parlamento podría corresponderle y upyd

dicho y hecho se debatió se solicitó

que el grupo nacionalista no apoyó pero los otros dos puntos sí y por unanimidad de este parlamento vasco se aprobó un punto de la moción que decía el parlamento vasco insta al gobierno vasco a cumplir las recomendaciones incluidas en el dictamen aprobado el pasado día dos de octubre del dos mil catorce por el pleno de la cámara

respecto a los que una sentencia determine que se ha hecho un uso no

si el informe lo tenía a primeros de enero señor barrio podría parecer lógico que si eso según usted modificaba sustancialmente la causa

o han pasado otras cosas entre enero y mayo momento en que se presentan la interpelación y esta moción

cuándo es el mejor momento de que un parlamentario sustancie un asunto ante el pleno

sobre un retraso al que en principio no le encuentro motivación objetiva y es cuando pensé que había dos situaciones nuevas que se habían creado ente enero y mayo una

a las puertas de una campaña electoral e hiriko resucita siempre que hay una campaña electoral y dos que dos exalcaldes de gasteiz y miembros del pp habían sido sentenciados por el propio tribunal español de cuentas públicas

si lo que pretende con esta moción destapar una sentencia en carne propia o sacar tajada electoral

sabemos a lo que venimos sabemos que estamos debatiendo y entramos en el famoso combate del y tú más pero si lo niega que me lo va a negar

aunque yo me quedaré con la primera reflexión que no es otra que esta moción es exclusivamente de carácter oportunista efectivamente

por todas las administraciones públicas y efectivamente detecta algunas posibles irregularidades

a la detección de otras posibles irregularidades por parte del tribunal vasco de cuentas

encontró fundamentalmente irregularidades genéricas de las ayudas del programa etorgai y no imputables en concreto al proyecto hiriko y lo hizo por unanimidad

respecto a las ayudas o al informe sino a que no se le pedía al tribunal vasco de cuentas la posibilidad

es decir el gobierno vasco ha analizado las ayudas otorgadas ha detectado errores y ha solicitado la devolución de esas ayudas

las que por cierto se están adoptando y ahora el tribunal español de cuentas detecta posibles irregularidades elabora recomendaciones muy similares a las del tribunal vasco de cuentas y a usted se le ocurre que el gobierno pida la devolución de todo por qué si hace solo un año

pedíamos que se solicitara la devolución de lo que una sentencia señalara que hubiera sido un uso indebido de las ayudas qué ha cambiado si todavía no ha habido una sentencia o ya considera usted que el informe del tribunal español de cuentas es una sentencia

ustedes por ejemplo no consideran ni sentencia definitiva lo de alonso y maroto como que para el informe preliminar

encontrará que ante todas las posibles acusaciones el gobierno vasco además

de cuestiones de carácter técnico que dan explicación a la totalidad de esas posibles irregularidades detectadas otra cosa es que no las atiendan lo cual puede entenderse por estrictas razones de carácter técnico que parece que también son interpretables o

porque el responsable de emitir tal informe sea alguien contrario a los intereses del pnv que también podría ser en cualquier caso y poniéndonos en lo peor

determine que todos los errores detectados por el tribunal español de cuentas son ciertos y una sentencia firme determine que hay que devolverlos pues oiga

si usted lee detenidamente el informe del tribunal español de cuentas

encontrará errores en cantidades concretas de partidas concretas pero no encontrará una descalificación

si hace un año nos pusimos de acuerdo en que el gobierno solicitara las cantidades que una sentencia determinase como incorrectamente gestionadas nos mantenemos

en tanto nada ha cambiado salvo un informe del tribunal español de cuentas que para nada es una sentencia nosotros puestos a comentar

quizás sí ha cambiado una circunstancia y es que estamos en campaña electoral pero eso para las formaciones políticas serias no debería ser un motivo para modificar una solicitud al gobierno de tal calibre el pnv en definitiva solo negoció

con el gobierno español no la dio ni la gestionó el pnv

ni otorgó ni gestionó una ayuda que se le dio a hiriko por parte del gobierno vasco el pnv no negoció ni otorgó

que por cierto también critica el tribunal español de cuentas y es el pnv

quizás van a subir el tono a medida que se acerque la campaña electoral y será el pnv el responsable de todos los proyectos de investigación que fracasan en euskadi

de la campaña electoral es el pnv que hace fracasar todos los proyectos de investigación en este país el responsable de que en euskadi no tengamos un premio nobel no sé de física o química por ejemplo

eso sí todo el que puede y si es del partido popular mejor se saca

maroto las imágenes de maroto de alonso de andrés

con esos proyectos que ni financia ni gestiona el pnv

en conclusión toda la cámara estuvo de acuerdo

ha pasado un año y no ha habido sentencia luego nosotros seguimos pensando lo mismo

un año salvo que hay elecciones circunstancia que usted señor barrio ha aprovechado para intentar escamotearnos convirtiendo el informe de un tribunal en una sentencia pero le aviso ande con cuidado y no se vaya a chinar que como dijo

el mayor peligro de engañar a los demás es que termina uno
inevitablemente por engañarse a sí mismo mucha gracias eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

señor tellería en principio de su intervención ha hecho referencia a la comisión de investigación y ha dicho

del caso hiriko del caso epsilon del caso de miguel o de otros casos pues la actitud del

al partido nacionalista vasco mire señor tellería las conclusiones

para dañar al partido nacionalista vasco el partido nacionalista vasco se dañó él solito apoyando proyectos

imposibles sin justificación sin aportación de dinero privado sin solvencia sin planes de viabilidad sin nada de nada señor tellería usted lo sabe y usted lo comprobó en la comisión de investigación

los representantes de los trabajadores de los que nos dijeron aquí en relación con el proyecto hiriko qué me dice

de asociaciones que participaban en el proyecto hiriko que no fueron capaces de justificar nada de nada de lo que en ese proyecto se actuaba es decir ese es el elemento fundamental no trate

trate de desviar la atención yo creo que el que trata de confundir en este tema es usted con otros asuntos que tienen su relevancia y que están ahí pero yo no voy a entrar en la provocación usted habla de los tiempos estamos ahora en precampaña y de que sale el proyecto hiriko pero señor tellería y el señor

ayer que la diputación foral de álava va a abrir los expedientes en relación con la recuperación de los dineros otorgados en relación con esta cuestión

un parlamentario que el otro día interpelé a la señora consejera y que

y fruto de la respuesta y de la interpelación en relación con una cosa que no me resultó satisfactoria pues he presentado una moción que está ahí pero bueno

de enero salió el informe del tribunal de cuentas se ha analizado pero desde entonces han pasado muchas más cosas señor tellería también tiene que recordar

el propio tribunal de cuentas ha seguido actuando en los expedientes de reintegro

habido escritos en relación con el abogado del estado con el ministerio en relación con la personación con la calificación de la quiebra culpable ha habido

del propio fiscal de los propios fiscales señor tellería

como para que nosotros pidamos en nuestra función normal de control del gobierno que el gobierno recupere todas las ayudas concedidas

dos mil once y dos mil doce que usted los conoce también es que todos estaban mal

y había gastos sin justificar no había garantías no había solvencia

de dinero privado señor tellería y fallaron y el pnv falló

se equivocaron con esos proyectos pero sea humilde y reconozca que eso fue así y nosotros hacemos nuestra labor y pedimos al gobierno que pida la devolución el gobierno de españa ya lo ha hecho

pues que proceda el gobierno vasco en relación con las enmiendas

su enmienda para mí es un poco insuficiente

yo creo que es insuficiente la diputación foral de álava y el gobierno central ya han tomado medidas

porque las administraciones cuando hay programas que fallan en relación con los dineros que da no necesita una sentencia judicial para empezar a pedir que se le devuelva el dinero son procedimientos

usted lo sabe usted los conoce que lo hacen todas las administraciones la municipal la foral las autonómicas la estatal

que vistos los informes que hay del tribunal de cuentas vistos los informes que hay objetivos fallido sobre el proyecto fracasado sobre la desaparición de dinero público en sueldos en viajes en dietas en supuestas contratación es de ingenieros que nadie conoce

mucho más claro que su enmienda que se queda un poco detrás si no aprueban la nuestra que yo le pido que haga una reflexión y que la aprueben porque yo creo que es

la moción que hemos presentado yo creo que es lo fundamental y si la diputación foral de álava y el gobierno central

porque conociendo al señor tellería seguramente

decía usted que claro el tema hiriko

el resto yo creo que las elecciones según usted para nosotros es una oportunidad para el partido nacionalista vasco está claro que es un negocio y sobre todo los resultados de las elecciones generales ahí aparece el negocio cuando usted nos dice no hay manera de defender o que no podemos defender que no sea más que un proyecto fallido a mí me vienen a la memoria por lo menos otros dos proyectos fallidos que fueron negociados por su grupo parlamentario en madrid

y otro es el de pasaia es que no dan una es que el problema empieza a ser cuando la manera

encontrar contratos para las personas que son allegadas al partido nacionalista vasco y ahí la cuestión el problema

el problema de todo esto recae en la asociación sin ánimo de lucro

de lo que en un principio era pública nace de la unión de varios ayuntamientos no voy ni a citar los nombres de los alcaldes que la crearon ni los voy a citar

en el devenir acabó siendo lo que veníamos denunciando unos cuantos que es una empresa de conseguidores es decir allí donde hay un ayuntamiento del partido nacionalista vasco me podría jugar la mano a que fueron estos señores con un proyecto me podría jugar la mano y es más

casi con seguridad que el ayuntamiento de gasteiz también tiene o tuvo en su momento

y todo bajo un paraguas de supuesta innovación desarrollo etcétera denokinn nació

vamos incluso a hacer que los alaveses financien un proyecto

que se financiase de una manera que no tenían porqué justificar absolutamente nada y ese es su modelo así es como consiguen ustedes las cosas

que llegasen a tener ese dinero en las manos siguen en cargos de responsabilidad algunos de ellos

aquí nadie dice nada ni se mueve nadie dentro del partido nacionalista vasco

sino qué personas estaban detrás de la empresa de conseguidores

que es denokinn y ahí se ve quienes están y son altos cargos del partido nacionalista vasco personas de cañerías personas que tendrán que demostrar cuál es su función porque a nivel empresarial y a nivel de ningún tipo aportan absolutamente nada

a través de su influencia a entrar a todas las administraciones y llevarse el dinero calentito

sí gracias presidenta es curioso esto de
electorales que se suelen invocar para criticar alguna iniciativa de distintos grupos cuando esas iniciativas no nos gustan o nos hacen daño en el caso de la supresión del aforamiento punto que hemos debatido anteriormente por parte de algún grupo se me ha acusado de lo mismo es que estamos en precampaña electoral

este parlamento vasco no solamente durante la campaña electoral a las elecciones generales sino incluso meses antes tiene que paralizar su actividad porque no se puede proponer

que es el tiempo durante el cual los principales partidos políticos llevan en campaña electoral

tiene que continuar tiene que seguir su ritmo y por otro lado cuando alguien dice que usted plantea esta iniciativa porque está en campaña electoral se entiende que esa

beneficia a unos y perjudica a otros y entonces en este punto el partido nacionalista vasco debería explicar por qué esta iniciativa en concreto le perjudica es decir si ustedes tienen argumentos de peso que expliquen su voto en contra a la iniciativa del señor barrio y además teniendo en cuenta que son muy hábiles dialécticamente no deberían tener ningún miedo

para hacer ustedes campaña electoral votar en contra de la iniciativa del señor barrio de todas las demás enmiendas y poder explicar a la ciudadanía de que esto es una inmensa falacia de toda la oposición representada por varios grupos no el parlamento vasco

también en precampaña electoral y esto es una cosa que hemos defendido varios grupos durante los últimos tiempos también cuando no había campaña electoral y esta es una posición política que ha sido defendida también por el grupo popular por lo tanto me parece que la mantenga yo no sé si la presenta el señor barrio por razones electorales evidentemente al partido popular como a todos los demás nos interesa ganar cuantos más votos mejor

y usted tendrá que explicar más bien las razones por las cuales vota en contra de esta iniciativa yo no sé si es por razones electorales o si es por la situación en la que se encuentran

lo que sí se es que upyd va a defender lo mismo que ha defendido en los últimos tiempos porque usted señor tellería a parte que debería reconocer que en los últimos tiempos hemos conocido algunas cosas y ha habido algunas novedades como el análisis del tribunal de cuentas

las declaraciones del fiscal etcétera nosotros

inicialmente planteábamos lo que planteábamos que era la petición al gobierno para la recuperación

al margen incluso de que hubiera sentencia judicial teniendo en cuenta todo lo que ya en ese punto sabíamos fue lo que decía nuestra moción ciertamente como yo soy

ante otros grupos y en concreto ante el grupo socialista para incorporar

finalmente esa transaccional que usted ha leído y que hace referencia a la necesidad de que una sentencia determine que se ha hecho un uso

de manera coherente ciertamente el grupo socialista recoge en su enmienda y de totalidad pero nuestra posición inicial era esa pedir la devolución de las ayudas sabiendo lo que sabíamos entonces y con más razón

por eso vamos a apoyar la moción del grupo popular y en el caso de que no salga por eso vamos a votar a favor de nuestra enmienda es el partido nacionalista vasco

para nada los que dejaron hacer al partido nacionalista vasco también son responsables los que habitualmente han dejado hacer al partido nacionalista vasco en esta comunidad también son responsables el gobierno socialista de zapatero que se dejó chantajear o quiso dejarse chantajear por las presiones del partido nacionalista vasco también es responsable son varios los responsables pero en este caso concreto estamos pidiendo la devolución de unas ayudas y esta

al gobierno vasco pero no es el único responsable aunque sí que es responsable en fin creo que

que el grupo nacionalistas vascos durante todo este tiempo ha sido el partido menos contundente en relación a esta cuestión y creo que deberían actuar de forma

es decir puesto que son militantes de su propio partido político los que están bajo sospecha lo razonable es que ustedes con su voto disiparan cualquier duda o al menos disimularan mejor puesto que militantes suyos son sospechosos

actuaciones indebidas ustedes deberían ser los primeros

todas las actuaciones necesarias para aclarar estos hechos y también para recuperar las ayudas pero es posible que vuelva a ocurrir lo que tantas veces ha ocurrido en otras ocasiones que el grupo socialista y el grupo de nacionalistas vascos se unan finalmente en la votación

por el grupo socialista puede ser que esto finalmente ocurra eskerrik asko maneiro jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

está usted hoy empeñado en pedir a todos que voten que no a todo para así diferenciarse usted me

de las razones electorales presentando enmiendas mociones es el campeón le entiendo tiene que buscarse un hueco en una selva muy grande y es usted

mire la comisión de investigación no perjudica al pnv pretendía perjudicar al pnv por eso nos opusimos era lo que pretendía pero bueno y lo que nosotros hoy intentamos precisamente en el punto anterior

no voten ahora porque hace un año votaron que no sigan votando que no pues mire yo soy coherente

vote lo mismo que votó hace un año que es lo que voy a hacer yo votar exactamente lo mismo que voté hace un año exactamente lo mismo porque no ha cambiado nada no ha cambiado nada porque el tribunal español de cuentas insisto hace un informe

sí ha pedido ahora ha empezado un trámite para pedir la reversión de unas ayudas pero de todas no de las que él encuentra fallos de las que él encuentra fallos el tribunal qué es lo que hace la diputación foral de álava por qué lo cuenta ayer ramiro gonzález porque el señor de andrés le pregunta y le contesta y le dice oiga he pedido

robot pero no el resto de ayudas que dio el partido popular a hiriko o sea que no

es un informe bien pero no tiene el gobierno vasco porqué pedir porque no está de acuerdo en lo que solicitan no está de acuerdo

en un alarde de estudio de análisis a fondo y de objetividad dice en el transcurso del proceso de evaluación de la solicitud presentada por el consorcio

siete de sus diez integrantes con una participación en el presupuesto del cuarenta y cinco por ciento pese a esta circunstancia la propuesta del órgano evaluador

lo cual no se considera adecuadamente fundamentado liquidado fenómeno un análisis

del tema para decir que no oiga un poquito más de seriedad es lo que en el informe de réplica del gobierno vasco es lo que hace pedirle un poquito de seriedad y decirle oiga eso es suficiente a nosotros nos valía y además le voy decir una cosa a ver si se aclara aquí las cosas el pnv dio esa ayuda

el pnv dio alguna de esas ayudas ninguna

a defender a ultranza que no se pida la devolución porque el gobierno vasco actual ha analizado las ayudas y cree que dentro del programa etorgai están bien dadas señor barrio están bien dadas y todo el mundo dice el fiscal el fiscal yo les quiero recordar una frase que dijo

a la denuncia del fiscal de uno de los asuntos de la denuncia del fiscal que era delito de fraude a las administraciones le dijo esto resulta insostenible que los hechos descritos en la querella puedan incardinarse en un delito de fraude a la administración del código penal ni la más imaginativa de las ingenierías jurídicas permite la interpretación

y me retrotraigo más cuando en epsilon el fiscal

del parque tecnológico aquí todo el mundo pidió cabezas cuellos en qué ha quedado en solo el presidente de momento el resto sobreseído y aquí nadie ha venido a decirnos

yo creía que el fiscal dijo el fiscal dice muchas cosas y los jueces dicen otras y nosotros esperamos y el gobierno vasco ha visto todos los informes y ha dicho oiga hemos analizado las ayudas etorgai que se dieron

que me los quedo y no se los doy estos treinta y siete mil euros que están malgastados y

lo ha hecho y usted lo sabe y se lo ha contado pues de momento es lo que han encontrado que es y eso se lo han contado por escrito por verbal

yo solo una cosa nosotros no queríamos que hubiera comisión de investigación por lo que le he dicho porque había una pretensión política y la pretensión política se demostró cuando ustedes

obviaron el informe del tribunal vasco de cuentas públicas

solo no haber considerado que decía que estaba correcto hecho significaba que eran subjetivos que iban buscando víctimas y por tanto eso quedó de esa manera demostrado

si sabían ya desde in illo tempore que era un proyecto fallido por qué de andrés alonso maroto y soria se sacaban esas